excepcional una situación de la cual el parlamento no es ajeno en absoluto no es momento ni de perder el tiempo ni de enredarse en debates

este parlamento debe responder sin duda a las demandas ciudadanas y para ello debemos garantizar el pleno funcionamiento de esta cámara garantizar el principio de representación no podemos permitirnos el riesgo de paralizar la actividad parlamentaria

cuestión de ineficacia a la hora de establecer las herramientas reglamentarias que nos permitan desarrollar actuar y poner al servicio de la ciudadanía y de esta cámara todo lo necesario

debe ser garantizando plenamente las medidas sanitarias para que desarrollemos las labores de debate control e impulso político más necesario hoy que nunca

esta legislatura representará un reto para esta cámara en tanto en cuanto no superemos la presente situación tampoco tengo ninguna duda y todas los parlamentarios y parlamentarias representados en esta cámara de acuerdo a nuestra responsabilidad pondremos de nuestra parte para estar a la altura de las circunstancias y de lo que se merece la sociedad vasca que parecían en otro momento intocables como la delegación de voto o el uso de herramientas telemáticas en el día a día parlamentario son absolutamente indispensables en estas circunstancias el parlamento es sin duda un servicio esencial para la sociedad vasca por eso debe

condiciones de acuerdo con el texto que presentamos los grupos firmantes impulsamos un trabajo realizado conjuntamente con los servicios jurídicos de la cámara a los que quiero agradecer especialmente su trabajo horregatik eta beharrezkoa den moldaketa hau aurrera eman behar dugulako

neurriak hartu behar dira y eso es lo que hemos acordado los grupos proponentes medidas excepcionales no sin antes dejarnos pelos en la gatera

a un acuerdo un acuerdo para garantizar el derecho de participación política todos los parlamentarios y parlamentarias y para poder ejercer con garantías

circunstancias excepcionales la labor de control e impulso al gobierno que es lo que define entre otras cuestiones

eskatzeko este es un acuerdo necesario a la vez que sencillo y lógico creo que somos realmente unos privilegiados y privilegiadas porque el daño que la covid diecinueve ha hecho a esta sede parlamentaria

con mascarillas con geles con mamparas y con un acuerdo así de rápido y sencillo mucho más complicado va a ser hacer frente a las consecuencias que el virus ha ocasionado a la ciudadanía

al sistema sanitario al educativo al sistema de cuidados al primer sector al tercer porque aquí es realmente donde habrá que demostrar

buenos días gracias señora presidenta es euskal talde popularra ciudadanos el grupo parlamentario

lehendakari consejeras consejeros buenos días a todos con brevedad y saludando en esta primera intervención ante el pleno en sesión ordinaria especialmente a las nuevas compañeras y nuevos compañeros mi grupo popular

su conformidad en términos generales con la propuesta de esta proposición de ley nos hubiese gustado haber podido estudiar con algo más de calma su contenido y haber podido hacer o debatir alguna propuesta que nosotros considerábamos

pero no ha podido ser en esta ocasión estaba claro que era necesaria una reforma del reglamento en lo referido a la

el voto telemático las sesiones telemáticas hemos visto la incidencia en el trabajo parlamentario de los efectos de la pandemia y el complicado y lamentable discurrir de la diputación permanente en estos últimos meses ha puesto entre otras cosas de manifiesto la necesidad de clarificación y orden en cuestiones que afectan al funcionamiento de la labor representativa de la cámara y al control y al impulso de la acción del gobierno en todo momento en cualquier caso y por que quede constancia es una reforma insuficiente en relación con las necesidades de agilización de control de impulso de garantías

pero entendemos que la aprobación del punto quinto del orden del día permitirá seguir trabajando en la reforma reglamentaria más a fondo también podemos

ni en la propuesta en donde se hace mención a los artículos ciento tres y ciento seis relativos al procedimiento de urgencia y a la lectura única

a la disposición adicional primera de parlamento que es precisamente la que se refiere a la reforma del reglamento es una cuestión pero es llamativa su ausencia también mi grupo planteó por escrito dos cuestiones con respecto al artículo setenta y cinco bis de la propuesta por un lado consideramos que

deben de hacerse referencia expresa a las de la diputación permanente más que nada para evitar dudas hemos visto funcionamiento distorsionado de la diputación permanente en los meses pasados

no se ha aplicado ni a las sesiones de la diputación permanente ni a su funcionamiento lo establecido en el reglamento para el pleno

de ese artículo nos parece demasiado inconcreta o amplia para justificar la celebración de sesiones no presenciales entendemos que debiera haberse hecho una referencia a que esas circunstancias extraordinarias supusieran restricciones en la libertad de movimientos o en el derecho de movimiento de los parlamentarios y las parlamentarias bien son algunas cuestiones que efectivamente encontraremos

porque hay que tomar esta decisión pero estas entre otras muchísimas cuestiones las podremos abordar si se aprueba se constituye la ponencia a la que se refiere

el punto quinto del orden del día de hoy nada más muchas gracias y votaremos a favor eskerrik asko

mesedez sí es que todo lo que sea

creo adecuado además adaptarnos a las nuevas situaciones que estamos viviendo

no cabe duda que tenemos que evolucionar en la medida en que nos sea posible a un entorno laboral que nos permita seguir ejerciendo nuestras funciones y obligaciones aunque situaciones excepcionales como la que hemos vivido con esta pandemia modifiquen nuestra forma de vida

para nuestro grupo parlamentario para elkarrekin podemos izquierda unida las medidas que se quieren adoptar en la lucha contra el covid

nosotros hemos suscrito una transacción con ellos nosotros pensamos que son de dos tipos por un lado medidas de carácter tal vez más coyuntural que no estaban en la agenda de nadie hace unos meses y medidas estructurales que necesita

y a las que el gobierno vasco en nuestra opinión viene haciendo oídos sordos hace tiempo algunas medidas urgentes o tal vez

relacionadas con las pruebas pcr las estrategias de rastreo por supuesto con la información la concienciación y las medidas de prevención

para el gobierno para cualquier gobierno tenemos que señalar que están fallando porque no se están dotando de recursos suficientes ni recursos técnicos ni recursos humanos

no es solo la recogida de muestra que vemos en el teleberri el trabajo realizado por las y los técnicos de laboratorio es fundamental preparación de muestra extracción de ácidos nucleicos técnicas que son muy complejas y que requieren un gran esfuerzo que en estos momentos está recayendo en pocos profesionales

y esto nos preocupa con una sobrecarga de trabajo para las y los técnicos de laboratorio en palabra de alguno de estos técnicos hace pocas semanas estamos haciendo guardias infernales de veinticuatro horas es urgente por lo tanto en nuestra opinión que el gobierno alivie sus cargas de trabajo porque si no además vamos a tener un problema serio en otoño e invierno con el momento de mayor impacto de las infecciones

y lo mismo se repite con las y los rastreadores cuya labor es fundamental para el control de la expansión del virus y de cuya escasez vienen advirtiendo al gobierno diferentes agentes entre ellos el colegio de médicos pero por otro lado como decía al principio necesitamos medidas y políticas que ya necesitábamos antes de la pandemia

medidas políticas que venían reclamando año tras año las y los profesionales de nuestra sanidad pública que se encontraban continuamente con el muro del gobierno vasco una de las cosas que están diciendo las y los trabajadores de osakidetza es que el gobierno vasco ni escucha

sobre la cantidad de cambios que requiere nuestro sistema de salud para no seguir por la senda de la degradación del mismo la nueva consejera dice que su puerta está abierta y muestra disposición al diálogo desde luego no vamos a ser nosotros los que no le demos una oportunidad también décimos

a rectificar en primer lugar una actitud de no negociación pero también la acción y las políticas del gobierno que no compartimos y sobre todo que no comparten

pero lo cierto es también que no estamos ante un nuevo gobierno sino ante la continuación del anterior

elkarrekin podemos izquierda unida vamos a procurar estar a su lado en las calles sí pero también aquí en el parlamento

que las y los trabajadores de osakidetza estén diciendo honaino heldu gara no es

ha venido a reventar las costuras de un modelo de sanidad pública que venía siendo adelgazado maltratado y castigado por externalizaciones y por la inadmisible temporalidad estructural que sufre un modelo producto de una acción de gobierno un modelo

no lo décimos nosotros lo han dicho todas y todos los representantes

que han pasado por esta cámara nuestra salud y el combate contra el virus depende

por eso para elkarrekin podemos izquierda unida la primera medida que debe adoptar el gobierno en la lucha contra el covid

atender sus planteamientos sus posiciones sus advertencias y sus críticas sentarse a escucharles pero sentarse también a atenderles y a negociar con ellos

por eso planteábamos en nuestra enmienda original lo primero de todo que el gobierno aborde de manera urgente una negociación con los sindicatos de la sanidad pública sindicatos que no solo quieren hablar de las condiciones laborales de las y los trabajadores lo cual

la calidad del sistema depende sobremanera de esas condiciones y eso parece que no lo quiere asumir el gobierno pero los sindicatos quieren hablar también del propio modelo de sanidad pública y creemos que aquí el gobierno también debe negociar y hablar con ellos se deben

de la mano de las y los trabajadores porque pensamos que son los que mejor conocen las debilidades y las carencias del mismo

buscan en nuestra opinión la consecución de una sanidad pública potente y digna una sanidad que disponga de los profesionales necesarios para la población de euskadi profesionales

con los recursos propios suficientes para evitar listas de espera sin derivar pacientes al sistema privado y buscan un modelo que no adjudique servicios innecesarios al sector privado

y mucho menos negocia con nuestras y nuestros profesionales sanitarios porque no comparte ese modelo

durante la pandemia hemos salido a aplaudirles durante meses todas las tardes en una demostración colectiva de reconocimiento y agradecimiento a su esfuerzo y a su sacrificio y nos están diciendo que están exhaustos que necesitan cambios que ya venían reclamando con anterioridad

o que llegaremos a un punto de no retorno no puede ser que lo que se encuentren como respuesta sea lo mismo que han estado encontrando como respuesta a los últimos años la nada hay que garantizar una plantilla estructural adecuada y la suficiencia de personal y eso pasa por revertir de manera acelerada la tasa de interinidad

en esta legislatura hay que garantizar una buena atención primaria que hoy no se da

y eso pasa por dedicar los recursos necesarios a la atención primaria en cada osi estos son cambios que hay que hacer en osakidetza como respuesta necesaria a la pandemia

son cambios que nuestro sistema de salud requería antes de la llegada de este virus son cambios que nos venían reclamando quienes mejor defienden la sanidad pública

cambios que se reclamaban y que no encontraban respuesta positiva en el gobierno vasco y en el departamento de salud que en ocasiones andaba más entretenido en otras cuestiones de momento las respuestas que dan los grupos que apoyan al gobierno no nos parecen

pero a pesar de la mayoría con la que cuenta el gobierno si no se atiende a los cambios que reclaman las y los profesionales de osakidetza

un serio problema la ciudadanía hoy en día es más consciente que nunca de la importancia de contar con un sistema público de salud digno potente y autosuficiente

ha tomado una importante conciencia del papel fundamental de lo público en la defensa

salud no estoy seguro de que el gobierno vasco haya tomado esa misma conciencia desde luego creo que con este tipo de iniciativas vamos a empujarle a ello ayer inauguraban

con ese nombre una de ellas en la intervención decía que no eran que los homenajes pueden estar muy bien pero que lo que están reclamando y lo que necesitan son cambios son recursos y que no se las maltrate

están en la calle no es por casualidad ni merece ni proviene de ningún contubernio de ningún tipo

las necesidades de nuestro sistema nosotros pedimos al gobierno vasco que los escuche que hable con ellos y que atienda sus propuestas eskerrik asko eskerrik asko hernández

dar la bienvenida al nuevo gobierno especialmente a la nueva consejera de salud a la señora sagardui a la que también le deseamos

en beneficio de toda la ciudadanía vasca queremos también

hacer un reconocimiento a la señora murga sí que es cierto que a lo largo de estos meses

hemos considerado que no se han hecho de forma acertada pero sí que queremos aprovechar y yo

el hacer su agradecimiento especialmente por su exposición pública por haber estado ahí

en soledad muchas veces nos ha llamado la atención esa imagen de soledad pareciendo la anterior consejera de salud dando cuenta de la información que correspondía a esta situación

al que usted está enfrente de él y sin duda también poner solución a muchas de las deficiencias que han quedado de manifiesto con la irrupción de esta crisis y sobre todo también llama la atención que este sistema en demasiadas ocasiones no se muestra lo efectivo que la ciudadanía vasca esperamos cuando tiene un presupuesto consignado de casi cuatro mil millónes de euros y un gasto por habitante

comunidad autónoma de los más altos de toda españa mil ochocientos uno euros por habitante gaur

el veintiocho de febrero se confirmaron los dos primeros casos en euskadi uno concretamente

esto llevó a que txagorritxu se convirtiera en el punto cero de los

hay que señalar que lamentablemente hemos tenido el número de profesionales sanitarios contagiados más alto de toda españa el primer contagio se produjo aquí y también la primera de un sanitario hay que decir que toda esta situación y el tener un foco en euskadi centrado en los hospitales creó

que determinadas actuaciones se adoptaron en un primer momento y a lo largo de los primeros meses por la consejera por el gobierno pues

una tranquilidad y sobre todo porque determinadas decisiones fueron acompañadas de demasiada improvisación muchas de ellas llegaron tarde cambios de criterios constantes

tarde cuando teníamos también el foco en las residencias falta de material de protección cambio de los protocolos también constantemente

el episodio de las mascarillas declaraciones a favor de sí de las mascarillas de no de sí de las mascarillas una cosa que nosotros hemos denunciado y nos ha parecido grave que ha sido el prescindir de un órgano específico que se creó en el año dos mil dieciséis por el consejero darpón para hacer frente a este tipo de situaciones como es el consejo asesor de enfermedades infecciosas y no solo

por un comité político creado ad hoc para gestionar

murga consideramos que ha habido demasiada improvisación como decía decisiones que han llegado tarde cambios de criterio

a una falta de plan específico cambios de decisiones que llevaron en un primer momento a convertir a los hospitales en el centro de la atención a las personas que se creían sospechosas de padecer

luego un teléfono que desde el principio no funcionaba y que los ciudadanos estábamos llamando continuamente y no obteníamos respuesta que llevaba también asimismo a que los ciudadanos fuéramos a los hospitales o luego el criterio que finalmente llegó de arbitrar o establecer unos centros de salud como puntos de referencia para atender a aquellas personas

por no decir la decisión de ir ciertamente de sobrados y prescindir los servicios que han sido satisfactorios de la unidad militar de emergencias como se ha visto en la comunidad de madrid

vidas esta pandemia en la última semana la cifra más alta de esta segunda ola hay quien dice que es la misma ola pero en otra fase y mil ochocientos setenta y cinco fallecidos hoy también conocemos

pues tendrá cosas más importantes también que hacer pero nos hubiera gustado que hubiera estado aquí presente

gustaría saber las razones de que no se convoque este órgano y también nos gustaría señora consejera que usted a la mayor brevedad posible pudiera diseñar

las personas que la van a acompañar en su equipo porque creo que sería deseable que bueno pues ese organigrama estuviera diseñado es equipo también para tomar las medidas pertinentes

pocos sin duda creemos que hay cosas que han llegado tarde el tema de las pruebas masivas

quiero recordar aquí el episodio de las residencias en este sentido tengo también que señalar que este grupo ha presentado una iniciativa para que se revise el modelo y se analice el modelo residencial en la comunidad autónoma vasca en colaboración con las diputaciones

que corresponda hay dos cuestiones imprescindibles que es aislar a la población asintomática previa identificación

se ha visto como uno de los principales problemas de la dispersión del virus cortar también las cadenas de transmisión y la necesidad de una visión que creo que es lo que ha faltado también integral o global y preventiva una visión que permita actuar con rapidez y de forma

como decía y voy a ir muy rápidamente por el tiempo que me queda dicho esto tenemos una iniciativa

nos hubiera gustado que se hubiera recogido algunas de las cuestiones que nosotros planteábamos en nuestra enmienda alternativa y sí que tengo que decir que

de los grupos que apoyan al gobierno partido nacionalista vasco y partido socialista pues nos parece que se queda

hace la autocrítica debida en estos momentos paso a explicar nuestra enmienda que al final es la que vamos a votar y obviamente la que paso como digo a defender indudable indudablemente consideramos

viendo que se ha prescindido absolutamente de él anteriormente hay que potenciar su papel y contar con dichos profesionales señora consejera y espero que eso así sea

que se revise la estrategia para la atención primaria en euskadi nosotros cuando se presentó esta estrategia la pasada legislatura ya anunciamos que era insuficiente que se parcheaban

esa estrategia no obedecía a medidas a corto medio y largo sin duda también es necesario reforzar y mejorar la atención domiciliaria los equipos del consejo sanitario y el servicio del ciento doce y también nos parece

un aspecto fundamental que es impulsar las políticas de salud pública para que podamos dar esa respuesta integral y necesaria en situaciones semejantes de pandemia

de la ciudadanía y a la educación para la salud y finalmente otra cuestión y acabo señora presidenta no me quiero

intervención creemos necesario que el gobierno mejore los mecanismos de seguimiento de los contagios contactos y brotes del virus

y creo señora consejera que si fuese necesario esta vez sí

de una ayuda que puede ser muy necesaria vemos cómo la comunidad de madrid ha vuelto a requerir la ayuda de los profesionales del ejército también ha habido una oferta por ahí del gobierno

del ejército formados expresamente para integrarse en los equipos de las distintas comunidades autónomas por lo tanto creo que esta iniciativa

gracias presidenta consejera vicelehendakari

en primer lugar y ya que estamos debatiendo sobre las medidas a adoptar para combatir la covid diecinueve en nombre de los socialistas vascos quiero manifestar

que no han podido superar la enfermedad y que han fallecido aquí en euskadi y también en el resto del estado decía la secretaria general de los socialistas vascos y actual vicelehendakari

que en este tiempo tan inédito que nos está tocando vivir es más necesario que nunca compartir esfuerzos compartir preocupaciones y compartir también las soluciones a los problemas que tenemos ya encima porque nadie estaba preparado para algo así

que combatir el coronavirus es una responsabilidad conjunta de las instituciones y de la ciudadanía aunque en diferentes niveles por supuesto

con las instituciones vascas con las diputaciones forales y ayuntamientos y también con el gobierno del estado por eso y desde la base de lo acontecido durante la pandemia en esta cámara los compromisos del acuerdo de gobierno y teniendo en cuenta las medidas que plantea la iniciativa presentada por bildu los grupos que sustentamos el gobierno hemos presentado una enmienda conjunta

la propuesta original realizada por la señora ubera adaptándola a los compromisos que el gobierno vasco ha adquirido en esta duodécima legislatura

instábamos al gobierno vasco y concretamente al departamento de salud a continuar atendiendo a criterios de transparencia y rigor publicando diariamente el boletín epidemiológico así como otro tipo de informes donde se reflejen los principales datos y la información más relevante de la evolución de la pandemia

a que dicha información se facilite sin tener que limitarse a una periodicidad determinada sino siempre que sea necesario y así venga determinado por la situación de cada momento en segundo lugar instábamos al departamento de salud a realizar en colaboración con los ayuntamientos

a través de la formación necesaria para adquirir hábitos que ayuden a evitar la transmisión y la propagación del virus en tercer lugar instábamos al departamento de salud a adecuar y formar a los equipos de recogida de muestras de pcr de rastreadores

consejo sanitario y demás personal que está realizando el seguimiento de los contagios y los contactos de las personas contagiadas a fin de que se pueda realizar la atención de forma

a que se avance en la estabilización de las plantillas de los servicios de salud pública así como a reforzar la atención primaria para que el servicio se pueda organizar a fin de que todos los profesionales puedan desarrollar su trabajo con calidad y ofrecer una atención adecuada a las necesidades generadas por la pandemia

en lo que respecta a la información y comunicación al primer punto que usted planteaba señora ubera y que también plantea la enmienda de los grupos que sustentamos al gobierno

son numerosos por no decir innumerables las informaciones y publicaciones que se han realizado desde el gobierno vasco y desde todos los ámbitos institucionales

ya llevan tiempo implementándose publicaciones e información pública por ejemplo sobre el uso de la mascarilla la actitud a mantener en los centros de trabajo

cómo actuar cuando se llega a casa si se utiliza el transporte público si se hacen compras se han publicado medidas de aislamiento domiciliario

un informe de vigilancia epidemiológica de covid en periodos de desescalada se publica el informe de vigilancia y control de casos y contactos estrechos en fase de escalada se publica el protocolo de vigilancia epidemiológica también son públicas las órdenes de la consejera de salud con las medidas excepcionales en materia de sanidad mortuoria en materia de limpieza y desinfección de superficies y otras medidas higiénicas de medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria una vez superada la fase tres

hay órdenes de suspensión de mercados tradicionales hay órdenes de medidas especiales para contención de brote epidémico y la extensión de medidas a mercados tradicionales

las instrucciones técnicas desglosadas de medidas de limpieza y desinfección de residencias geriátricas y otros centros sanitarios de lugares de concurrencia pública de viviendas y espacios comunes de viviendas y urbanizaciones de residuos en las viviendas de aislamiento domiciliario y de la vía pública y espacios públicos

la situación epidemiológica de euskadi por tanto se puede decir sin faltar a la verdad que bajo criterios de transparencia y rigor se han elaborado múltiples informes instrucciones órdenes consejos y boletines que dan información y datos de la pandemia y reflejan medidas y hábitos a seguir contra la misma

a la evolución de la pandemia y a las necesidades que van surgiendo a raíz de los rebrotes lo que los socialistas vascos consideramos como importante y fundamental es el mantenimiento del compromiso

con los principios de transparencia y rigor en una pandemia y crisis sanitaria inédita que requiere de datos ciertos y diagnósticos precisos para no errar

que la población adquiera hábitos que eviten la propagación del virus y de ahí que en nuestra enmienda instemos al departamento de salud a realizar en colaboración con los ayuntamientos

a través de la formación necesaria para adquirir esos hábitos que ayuden a evitar la transmisión algo que usted también ha planteado instamos también en nuestra enmienda al departamento de salud

el seguimiento de los contagios adaptando los mismos a las necesidades que vayan surgiendo para realizar una atención y un seguimiento de forma adecuada de forma eficaz a la coyuntura que se precisa en cada momento planteamos los socialistas vascos en nuestra enmienda conjunta un cuarto punto que engloba de alguna forma la pretensión de lo que ha hablado la señora ubera y algunos otros portavoces de los grupos parlamentarios y es que

y es el refuerzo de la atención primaria y la estabilización de las plantillas de los servicios de salud pública en el acuerdo de gobierno se establece el compromiso de consolidar y reforzar los servicios públicos entre ellos el de salud

nuestro sistema sanitario para dar una respuesta adecuada a las nuevas amenazas de salud pública que se ciernen sobre la ciudadanía vasca

y por eso hay que reforzar la gestión pública del sistema el reconocimiento por parte del gobierno vasco de las deficiencias del sistema que ha puesto de manifiesto esta pandemia supone un primer paso importante para plantear con realismo y humildad

con la ciudadanía vasca en el ámbito de la salud pública de ahí que para garantizar esa salud pública se plantee como eje de acción del gobierno el refuerzo de la salud a través de cinco compromisos primero reforzar la atención primaria avanzando la integración asistencial

tercero desarrollo de un ecosistema propio de investigación sanitaria

ligado al ámbito sanitario cuarto ampliar y renovar y consolidar las plantillas y mejorar la formación y el reconocimiento a los y las profesionales de la salud

el compromiso de una salud más cercana y al servicio de las personas la enmienda planteada por los grupos nacionalistas y socialistas vascos recoge la propuesta de euskal herria bildu pone de nuevo de manifiesto la voluntad y el compromiso del gobierno vasco de reforzar y adaptar nuestro sistema de salud a la coyuntura actual y de cara también

en esta pandemia las últimas propuestas de su iniciativa original señora ubera se integran en los compromisos del uno al cuarto que están planteados en el acuerdo de gobierno y por tanto ante la asunción por nuestra parte de la práctica totalidad de los contenidos de su iniciativa original

que nos realizaba para hacer una transacción ocho nuevas propuestas que era

parlamentarios y supongo y quiero pensar que es un ejercicio de buenismo para con sus compañeros y compañeras de oposición

quedar bien y que nadie se sienta excluido con su iniciativa pero que hace inviable cualquier acuerdo porque se basan sus propuestas en datos que no están contrastados que para nada coinciden con los que dispone el propio sistema de salud esta no va a ser la única iniciativa que debatiremos en esta cámara relativa

de salud sobre qué respuestas son las más acordes a la coyuntura en la que nos encontramos para entonces espero que la consejera y su departamento hayan podido

con el objeto de debatir entre todos y buscar entre todos las soluciones más idóneas para esta circunstancia que estamos viviendo y para el medio plazo que vamos a vivir gracias

eta ez dago deseginda ezta ere gure osasun sisteman desde que allá por el mes de febrero se detectaron los primeros casos de covid el gobierno vasco ha tenido que reorganizar nuestro sistema de salud para hacer frente a las necesidades sanitarias que se derivaban de la pandemia pues como todos los sistemas del mundo

que nuestro sistema sanitario construido entre todos y todas durante estos años ha demostrado la suficiente fortaleza para hacer frente a esta nueva situación

clara la necesidad de reforzar nuestro sistema sanitario para dar respuesta adecuada a las nuevas amenazas de salud pública que se ciernen sobre todos nosotros y así queda recogido también

etengabe momentuan momentuko beharretara egokitu ditzala es fundamental el seguimiento de las personas contagiadas porque si bien la prevención es importante desgraciadamente

todos los contagios por lo tanto una vez que se han producido el seguimiento a las personas contagiadas y a sus contactos más estrechos es fundamental para cortar la transmisión del virus y es básico para ello contar con los medios humanos y materiales suficientes sin ninguna duda

la labor de los rastreadores para localizar efectivamente todos los contactos el aislamiento pero también es importante en este punto y sin querer responsabilizar a la ciudadanía que parece que es lo que se nos achaca también como que estamos poniendo

pero yo creo que todos a estas alturas sabemos que todos nosotros algo tenemos que hacer para no contagiarnos o para evitar el contagio o para evitar la transmisión

pues hay que acudir y si se nos dice que luego tenemos que hacer una cuarentena y tenemos que estar aislados lo tenemos que cumplir porque si no los protocolos desde luego sin la colaboración de todos y todas no valdrán para mucho eta

que para la respuesta adecuada a la pandemia la integración de los dispositivos de salud pública también en los servicios de atención sanitaria es necesario y

de facultativos y de enfermería y también desburocratizando la labor de este personal

los perfiles de las personas que tienen que estar en esa atención primaria y la implantación de nuevas tecnologías para la detección y seguimiento de los casos covid diecinueve también la apertura de nuevos centros de atención primaria

de los que lo necesiten y todo ya está también como compromiso recogido en ese acuerdo de gobierno y se irán materializando en los próximos meses y años gure taldeak

buenos días señora presidenta señores y señoras parlamentarias

algunas fortalezas y muchas debilidades cuanto más se ha exigido a la población esta ha respondido eficientemente colectivos profesionales como sanitarios bomberos policía ejército transportistas personal del supermercado han demostrado una profesionalidad fuera de toda duda

sin embargo por el lado contrario nos encontramos una clase política incapaz de enfrentar un difícil reto más preocupada por sus sillones que por los problemas de la calle poniendo sobre la mesa cuestiones como la convocatoria de elecciones o la reforma laboral cuando realmente

hemos visto cómo las circunstancias superaban al gobierno central asimismo ahora vemos cómo esas circunstancias también superan al gobierno vasco eso sí

mucho ego mucho interés personal y muy poco compromiso con la ciudadanía con los empresarios con los trabajadores con los autónomos sobre todo esta pandemia ha certificado el fracaso del actual modelo autonómico diecisiete protocolos sanitarios desconexión absoluta

es normal ver a una persona que vive en vitoria y va a trabajar a miranda de ebro o vive en logroño y trabaja en bilbao

que deberían ser del gobierno central necesitamos un guion común un abordaje nacional de un problema que es de todos los españoles el compromiso

sea de la misma calidad que la mejor de todas ellas por lo demás muy bien que se facilite información a diario aunque podría ser un poquito más sencilla de digerir

en especial cómo interpretar los mensajes siempre cambiantes cuando no contradictorios que si mascarillas sí que no o tal vez los guantes no pero sí

podemos estar de pie en una barra sentados no en la calle cinco seis es lo que confunde esto es lo que resta credibilidad a lo que el gobierno dice vamos que la mejor campaña que ustedes pueden hacer es aclararse y evitar

estabilizar las plantillas y reforzar la atención primaria creo que no es más que un brindis al sol porque además creo que son palabras sin contenido y sin concreción de hecho es uno de los primeros compromisos que todos los consejeros de sanidad y salud solicitan y dicen que van a cumplir cuando ocupan su cargo

y mal muy mal también que su compromiso sea solo el de formar a rastreadores cuando lo que necesitamos son más y hay muchos que están formados

dos mil militares el gobierno central a todas las comunidades autónomas aquí no ha llegado ninguno también una pregunta qué sucede con el radar covid

ya está traducida al euskera es evidente que en castellano debía de funcionar muchísimo peor

dagoela para seguir avanzando para fortalecer ze zenbat urte daramazkigu esaten

a los cinco minutos porque en realidad no quiero añadir demasiadas cosas pero sí que estoy un poco sorprendido por alguna de pues por las intervenciones de la señora berasaluze y de la señora corcuera por alguna de las cosas que han dicho porque dicen que

recoge todo lo que trae la iniciativa original del grupo proponente primero yo no entiendo que se presente una enmienda a la totalidad que recoge todo lo que recoge la iniciativa de un grupo proponente pero bueno y luego no entiendo que no hayan llegado ustedes a un acuerdo dice la señora corcuera la transacción a la que han llegado que hemos llegado

lo que supone es una especie de buenismo para recoger lo que otros grupos de la oposición han planteado que entiendo que se refiere a nosotros porque la transacción qué yo sepa

con ningún otro no sé algunas de las cosas que nosotros

las que les molestan que tienen que ver creo con algunas cifras y con algunos planteamientos que nosotros hemos defendido en la anterior legislatura

que vienen de viejo pero que son necesarias si queremos afrontar con eficacia la pandemia que es la iniciativa o el título de la iniciativa que se traía

quienes trabajan en nuestro sistema público de salud porque recoger generalidades es muy sencillo y nosotros y además creo que también lo hemos demostrado en más de una ocasión estamos dispuestos en ocasiones a firmar generalidades

a firmar generalidades cuando hay un historial cuando hay un historial en un tema concreto lleno de generalidades que luego no se cumplen por lo tanto creo que en estos momentos si el objetivo del gobierno o del departamento es real de negociar con las y los profesionales de nuestra sanidad pública y de avanzar en plantillas estructurales

en acabar con el exceso de externalizaciones de servicios con dotar adecuadamente la atención primaria como vienen requiriendo

hay que empezar a poner números y a adquirir compromisos no valen generalidades y puedo entender que a la oposición en el parlamento no nos den ni agua

con los sindicatos ayer decían que todavía no les había contestado la consejera a pesar de las buenas palabras

movilización vamos a ir viendo nosotros desde luego desde nuestra posición política lo que haremos en este parlamento también es empujar para que en estas cuestiones empiece
números concretos y se empiece a respetar de verdad lo que están pidiendo las y los profesionales de la sanidad pública eskerrik asko hernández jauna

que se han detectado a la hora de la gestión de esta crisis por parte

esencial hacer una mención expresa al papel del consejo asesor de enfermedades infecciosas hay que decir claramente que se ha prescindido absolutamente de este órgano sin una

ha sido entendido por el conjunto de la ciudadanía

órgano formado además por profesionales especializados en tratar este tipo

específicamente en el año dos mil dieciséis para ello esperemos señora consejera que usted rectifique en esta cuestión porque creemos que fue un error un error

con este consejo asesor de enfermedades infecciosas yo creo que hubiera sido valioso y hubiera ayudado a tomar decisiones quizás más efectivas y que no hubiera habido en demasiados momentos demasiada confusión por parte

ciudadanía vasca por otra parte tengo que decir a la señora corcuera a

en sus intervenciones no veo autocrítica veo incluso demasiada autocomplacencia falta de concreción también y falta de compromiso y creo

también es necesario hacer propuestas más concretas y proporcionar sobre todo certezas en un contexto

demasiada confusión en muchas de las actuaciones que se han puesto en marcha aparte del consejo asesor de enfermedades infecciosas nosotros

hincapié en todo lo que tiene que ser el equipo de rastreo creemos que hay que mejorarlo y obviamente pues ya entendía que

entender digo desde el planteamiento partidista de los grupos nacionalistas que no

por parte de eh bildu y podemos una referencia expresa también a contar con el servicio que en esta cuestión concreta ha ofrecido el ejército no creo que

recibir no puede ser negada como ya decía como pasó con la unidad militar de emergencias como decía este equipo sin duda hay que incrementarlo

identificar todas las personas que han podido ser contagiadas detectar los focos concretos y sobre todo

también las personas asintomáticas por lo tanto vamos a defender nuestra propuesta concreta creemos que es la que se ciñe

a los aspectos más delicados y a los aspectos que hay que tratar específicamente en este momento y por las razones que

de los grupos eh bildu y podemos y obviamente creemos que además siendo coherente

de todos estos meses pues no nos queda más remedio salvo que

de actitud y un cambio de posición pues votar en contra de la propuesta

socialista tendremos ocasión señora consejera de debatir sobre estas cuestiones yo también anuncio que pediremos la comparecencia del consejo asesor de enfermedades infecciosas creemos que la voz que no ha tenido a lo largo de todos estos meses pues es oportuno oírlo en este parlamento al margen también

a su primera comparecencia y esperemos porque esperamos que así sea y además tiene que ser así que usted para entonces tenga su equipo

lo haya presentado ya a la opinión pública antes de dicha fecha besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

sí gracias presidenta yo repito señora ubera los socialistas vascos coincidimos en muchas de las reflexiones que plantea su iniciativa y también en sus propuestas de resolución y por eso la hemos matizado y adecuado en nuestra enmienda para acompasarlas para acompasar esas propuestas a los compromisos del acuerdo de gobierno que hemos firmado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra ahora bien con su enmienda transaccional

bastante más lejos al ver nuestra enmienda la enmienda que hemos presentado conjuntamente ha caído en la cuenta que su iniciativa se le había quedado corta porque la aceptábamos prácticamente

señor hernández y en una suerte de trampantojo nos plantea ahora una transacción que no busca una posibilidad de un amplio acuerdo sino poner en evidencia a los grupos que sustentan al gobierno

y para intentar llegar a un acuerdo sobre las medidas para combatir la covid diecinueve para ese acuerdo riguroso

no pueden pretenderse señora ubera actos de fe basados en datos que no han sido contrastados como ha pretendido usted hacerlo en el día de hoy le reitero el compromiso de los socialistas vascos por reforzar la salud pública

la atención primaria eso es un compromiso concreto que está en el acuerdo de gobierno con su pleno desarrollo se pretende también en ese acuerdo de gobierno avanzar en la integración asistencial

la plantilla de personal facultativo y las plazas de enfermería interna residente y desburocratizando la labor del personal médico y de enfermería no me lo estoy inventando no es mi discurso está en el acuerdo de gobierno

por ampliar renovar y consolidar las plantillas mejorando la formación y reconocimiento a los y las profesionales de la salud también está en el acuerdo de gobierno para ello se convocarán cuatro mil plazas en ofertas públicas de empleo durante esta legislatura

se revisará la actual relación de puestos de trabajo para incorporar nuevas categorías profesionales e incrementar las dotaciones de aquellas que resulten infradotadas está en el acuerdo de gobierno

especialmente la detección seguimiento y tratamiento de enfermedades infecciosas

coordinado con el gobierno de españa y el organismo de coordinación de la unión europea trabajando además para una mayor integración y coordinación de los dispositivos de salud pública en el conjunto de los servicios de atención primaria está en el acuerdo de gobierno los cinco compromisos programáticos del gobierno para reforzar la salud pública

suponen en su desarrollo una ingente cantidad de acciones de programas y de planes en los que esperamos contar con sus reflexiones con las reflexiones de todos ustedes con sus aportaciones al igual que con las de los agentes del sistema sanitario vasco y que nos permitan no solo y ganar la lucha contra la covid diecinueve y superar esta crisis sanitaria sino también dejar preparado nuestro sistema de salud ante cualquier nuevo paradigma

también a impulsar las medidas que el ministerio de sanidad acuerde con euskadi como por ejemplo ha sido el caso de la declaración de actuaciones coordinadas del pasado nueve de septiembre que es un nuevo paquete de medidas acordado entre todas las administraciones para hacer frente a la pandemia provocada por la covid hemeretzi

a acuerdos más amplios que el que hoy hemos logrado pero la voluntad era clara por parte de los socialistas vascos con la enmienda que hemos presentado que era asumir la propuesta

a los compromisos del acuerdo de gobierno cuando usted ha visto que el acuerdo era posible ha vuelto a hacerlo ha huido ha dado el portazo se ha ido con otro grupo de la oposición será

puntual de este asunto ha dicho usted han traído papel no ha traído

sustentada en un acuerdo de gobierno y yo espero que de verdad

nos va a todos mucho porque nos puede ir hasta la vida gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

el cuanto peor mejor hori ya está como muy manido pero es que es verdad

del parlamento una iniciativa para comprometernos con el mantenimiento del empleo y también con el respeto

ante la intención manifestada durante los últimos meses de destruir puestos de trabajo por parte de algunas importantes empresas

los datos de la incidencia de la pandemia sobre el mercado laboral nos muestran los duros efectos y graves consecuencias que está teniendo la pandemia para la clase trabajadora aún con las medidas que han supuesto un dique de contención impulsadas por el ministerio

sin embargo muchas de las empresas que anuncian medidas traumáticas para las y los trabajadores se encuentran lejos de situaciones críticas

para mantener beneficios a pesar del constante declive

euskadi mantiene una estructura productiva diferenciada de otros territorios más castigados y más dependientes de sectores como el turismo al contar aún nuestra comunidad con cierto peso de sector

por esa razón los anuncios de despidos por centenares en empresas industriales que se han ido conociendo este verano pasado

y ocuparnos desde luego a elkarrekin podemos izquierda unida nos preocupan y nos ocupan

en una lucha que van a tener que dar y que ya están dando de la mano de sus sindicatos de clase son ya unas cuantas las empresas industriales que han anunciado

despidos de plantilla algunas de ellas empresas que son tractoras en sus respectivos entornos y que podrían considerarse además estratégicas empresas

como aernova y otras empresas además muchas de ellas creadas en el país vasco aunque sean hoy en día

no tenga nada que ver ni con el país ni con compromiso alguno con el mismo pero sobre todo se trata de empresas que han tenido enormes beneficios

se trata por lo tanto de empresas que estaban en una buena situación

obteniendo importantes beneficios y reparto de dividendos por ello pensamos que es inadmisible que después de obtener tantos beneficios estas empresas pretendan que cientos de trabajadoras y trabajadores pierdan sus puestos de trabajo y por lo tanto sus únicos recursos económicos que vean empeoradas sus condiciones de trabajo como parte del chantaje que se les hace esto supone además un nuevo golpe

vasca cada día más tocada a pesar de las promesas electorales en las recientes elecciones todos los partidos políticos

y también como herramienta para la generación de empleos de calidad sin embargo una vez pasada la cita electoral nos encontramos que ante los anuncios de grandes empresas industriales

el gobierno vasco reaccionaba con comprensión ante dichos planteamientos cuando no justificándolos de manera especial en voz de la consejera precisamente

una fijación con la bajada de salarios para afrontar cualquier cosa problemas coyunturales bajar salarios para evitar despidos problemas estructurales se pueden bajar salarios para evitar despidos hay que mejorar la competitividad de las empresas se puede hacer bajando

hablar de bajar salarios para invertir en formación es verdad que luego la consejera matiza no tiene que ser generalizado hay que ver cada empresa y tal hoy en la iniciativa que traemos y en la transacción a la que hemos llegado con el grupo eh bildu al señor casanova le agradezco la disposición a negociar no estamos hablando de pequeñas empresas familiares ni de empresas ahogadas por situaciones económicas previas que se ven abocadas al desastre

estamos hablando de importantes corporaciones que han tenido cuantiosos beneficios durante años que han contado con ayudas públicas

y que han otorgado importantes cantidades económicas a propietarios y accionistas pensamos que es del todo inaceptable incluso inmoral diría yo que quienes han obtenido importantes beneficios económicos de la actividad de la empresa y por lo tanto del trabajo de las y los trabajadores planteen ahora como primera medida ante problemas coyunturales

o que planteen recortes en sus salarios y en sus condiciones

la utilización de la situación y el contexto complejo surgido a raíz de la pandemia como justificación para plantear despidos bajadas salariales o empeoramiento de las condiciones de trabajo no tiene en realidad nada de novedoso solamente se utiliza en esta ocasión la pandemia como excusa

para hacer lo de siempre lo que se plantea también en otras ocasiones se pretende trasladar el coste precisamente a quienes menos obtienen de la actividad de las empresas a quienes más contribuyen a las mismas

a las y los trabajadores algunos de los ejemplos con los que nos hemos encontrado últimamente son en nuestra opinión bastante sangrantes itp plantea despedir a cerca de doscientos trabajadores y trabajadoras en bizkaia

una empresa que pertenece a un grupo multinacional que obtiene beneficios multimillónarios una empresa que a pesar de esos resultados plantea como solución a la situación generada por el covid despidos y recortes a los trabajadores no pensamos que esto no es aceptable

lo mismo pasa en tubacex uno de los líderes mundiales en la fabricación de aceros industriales

no solo así lo afirma sino que explicaba hace pocas semanas que el grupo está cada vez más fuerte y que la compañía ha experimentado una mejora importante en cuanto a posicionamiento de mercado decía él vendiendo cada vez más al cliente final y productos premium con valor añadido

materiales y proyectos según este consejero delegado la empresa tiene una buena liquidez permanente y una caja por encima de los ciento cincuenta millónes de euros sin embargo a pesar de esas declaraciones o mejor dicho a renglón seguido de las mismas

ajustes de plantilla es decir despidos así la empresa ha planteado despedir al menos a ciento cincuenta trabajadores pues no nosotros pensamos que esto no es aceptable

otra importante empresa que propone lo que la patronal llama ajustes

ayer me hacía cierta gracia aunque no es nuevo escuchar en este caso al portavoz

de la patronal aquí en euskadi hablar de la necesidad de adecuar salarios a la nueva situación siempre se usan

términos para intentar decirlo claramente cuando están planteando bajadas

elkarrekin podemos izquierda unida podría ser aumentar los salarios porque en general son bajos para el coste de la vida desde luego en euskadi

necesidades como por ejemplo la de la vivienda pero obviamente cuando la patronal habla de adecuar salarios a la situación solo se refiere a bajarlos y sobre todo siempre

aernova se mete en un prestamo de cuatrocientos millónes de euros de los cuales una cuarta parte pretende destinar pagar dividendos ahora plantea recortes

nosotros no lo entendemos pensamos que no es aceptable ese tipo de planteamientos en ese tipo de empresas y este parlamento pensamos que debería decir que no es aceptable eso es lo que proponemos a este parlamento hoy también el gobierno vasco que tiene responsabilidad directa en la larga cuesta abajo en la que se ha convertido nuestra industria debería decir que no es aceptable comenzar a cambiar no solo su política industrial con la cual se han perdido veinticinco mil empleos en los tres últimos años

sino también su actitud y posición ante estas prácticas donde los intereses del capital pasan como auténticos rodillos por encima de los derechos y las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora

sin embargo tenemos en nuestra opinión un gobierno que es extremadamente comprensivo con los anuncios de despidos con los anuncios de rebajas salariales o condiciones de trabajo y exquisitamente cómplice con las estrategias empresariales que suponen al final precarización o pérdidas de puesto de trabajo con el único objetivo de mantener las cuentas de resultados las tasas de ganancias de propietarios accionistas o de grandes grupos empresariales las y los trabajadores de nuestra industria en general y de estas empresas que he mencionado en particular

del parlamento y también del gobierno vasco un respaldo que en nuestra opinión brilla por su ausencia creemos que la mejor manera de que este parlamento muestre

con las y los trabajadores sobre los que acecha en estos momentos la amenaza del despido o el empeoramiento de sus condiciones laborales es ser contundentes y claros ante las intenciones de algunas empresas de utilizar la pandemia para mejorar su situación a costa de empeorar la situación de las y los trabajadores de las

creemos que la mejor manera de afrontar los problemas de pérdida de peso de los sectores industriales en nuestro país es también utilizar la capacidad de intervención pública en la toma de decisiones

en la toma de decisiones creemos que el gobierno vasco en vez de liderar la oposición a la fórmula de los despidos y recortes de derechos laborales

está siendo partícipe del chantaje que se hace a las y los trabajadores cuando se les dice

o serán responsables de los despidos o cierres empresariales

algunas empresas por eso pensamos que las y los trabajadores deben encontrar en este parlamento un respaldo contundente por eso traemos

que tiene esos dos objetivos por un lado obtener un respaldo contundente de esta cámara a las y los trabajadores ante los planteamientos de algunas empresas que nos parecen inaceptables no va a pasar porque no hay un acuerdo mayoritario en la cámara y nosotros lo lamentamos

van a sostener la posición y la actitud del gobierno respecto a esta cuestión y también pretendemos pretendíamos que este parlamento le instara al gobierno vasco

más decidida donde lo público jugara un papel importante donde lo público jugara un papel importante en la orientación y en la participación en la

va a ser entendemos que las mayorías que han conformado el nuevo gobierno van a preservar esa orientación del nuevo gobierno que es la misma orientación anterior estamos ante el mismo gobierno nosotros en cualquier caso elkarrekin podemos izquierda unida vamos a seguir trayendo aquí iniciativas que entendemos son positivas y que son de respaldo a las y los trabajadores porque nos parece que no es suficiente con mantener posiciones

más vulnerable que la otra donde no hay una correlación de fuerzas igual pensamos que hacer eso es en cierto modo respaldar a la parte fuerte de ese conflicto

algunas empresas que están ejerciendo unas malas prácticas eskerrik asko isiltasuna mesedez

guk filmetan bezala sailburuari galdetuko diogu dime algo que no sepa

estamos hablando de un puñado de empresas en crisis que son la avanzadilla

una situación que tendrá más consecuencias en eso coincido con la consejera porque es evidente y de hecho ya en privado tenemos conocimiento de que otras empresas y supongo que el gobierno tendrá todavía

de forma inminente van a entrar en una situación de este tipo en un primer momento me gustaría situar dos tipologías

el resto las del sector aeronáutico evidentemente padecen además de este contexto económico desfavorable global

añadidas aparejadas a la crisis específica que afecta de manera muy contundente al sector aeronáutico que ha visto desplomarse su cartera de pedidos es evidente que el sector aeronáutico vasco

ha venido creciendo más o menos a su manera sin que los gobiernos hayan hecho una apuesta decidida por él y este sector aeronáutico necesita un apoyo para transitar una auténtica travesía

en la cual se prevé que en un momento dado haya una recuperación del mercado

con la transición ecológica y demás pero en estos momentos tenemos que acompañar a las empresas del mundo aeronáutico para que hagan esa travesía tenemos que facilitarles flexibilidades en la devolución de los créditos o en el acceso a nuevos créditos y tenemos que habilitar también

operaciones de rescate de fusión de ampliación de capital poder estar en ellos también con dinero público y evidentemente también tenemos que exigir a estas empresas responsabilidad social

de la nueva cultura empresarial y luego ver cómo a las primeras de cambio las empresas utilizan a los trabajadores a su plantilla como un fusible que ante el primer sobrecalentamiento al primer subida de tensión se funde y se tira a la basura pues no no como ha

que han ganado cuatrocientos millónes de euros en los últimos años noventa y cinco millónes

no pueden plantear de buenas a primeras que la única solución es reducir de forma drástica y brutal la plantilla no me puedo extender por falta de tiempo pero tampoco en sidenor y tubacex se dan las condiciones objetivas para afrontar los procesos

sidenor pide un erte que es carta blanca durante quince meses para la flexibilidad absoluta y total en relación a la gestión de la plantilla

de la automoción que al menos a corto plazo parece que muestra síntomas de estar rebotando y por tanto es un erte injustificado y en el caso de tubacex cuando vemos cómo se dirige al accionista y cómo se dirige al trabajador vemos un nuevo caso

en este primer semestre incluso en el segundo trimestre de dos mil veinte que ha sido el momento

y vende cosas como que la deuda es asumible que está ligada a la financiación del circulante que no es una carga insuperable para la empresa eso le cuenta al accionista al trabajador le dice que el veinte por ciento a la calle quinientos empleados fuera hori ezin dugu onartu

la frase que importó de méjico aquella de si va bien mezcal y si va mal mezcal yo la miré en google y además tiene una continuación y si no hay remedio litro y medio pues bueno

bajar impuestos y bajar salarios en cualquier situación eso sí

en forma de ayudas de proyectos europeos o de otro tipo de subvenciones ahí están

para ayudar a las empresas en momentos de dificultad y también les sirven para ayudarse entre ellas y por eso queremos una fiscalía justa que permita el gobierno tener un músculo financiero para apoyar a las empresas

con la excusa con el pánico generado por el hundimiento de la economía se implementaron medidas de recortes de derechos sociales de forma generalizada y también

a la situación propia de las empresas sino aprovechando la situación general para llevar los recortes

en el mismo error desde el primer momento estaremos enfrente de estas medidas que aprovecharse de la situación
para establecer recortes en derechos de plantillas eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak corcuera

muchas gracias presidenta hoy es el primer pleno ordinario de esta

iniciamos un nuevo curso político muy diferente al que podíamos imaginar al finalizar la anterior legislatura por los efectos

del covid diecinueve que hemos sufrido durante este tiempo y que aún continúa entre nosotros hoy los ciudadanos están sufriendo la incertidumbre de la salud pero también de su futuro económico y de sus familias es por eso por lo que es muy importante que sigamos centrando y concentrando todo nuestro esfuerzo

en marcha la economía se trata de proteger y de avanzar esta pandemia y sus consecuencias son

en los últimos cuarenta años y va a marcar un antes y un después todos nos jugamos mucho la salud de nuestros mayores de nuestras familias

y el futuro del empleo y hay muchos frentes abiertos tenemos como objetivo salir

y de seguir avanzando pero no iniciamos esta legislatura partiendo de cero

los efectos sobre la salud y sobre nuestra economía desde el inicio de la pandemia hasta ahora las medidas de choque adoptadas por las instituciones han permitido

responder al peligro inmediato desplegando nuevos recursos para hacer frente a la crisis sanitaria con el fin de mitigar los impactos

y volver a la senda perdida por el impacto de la pandemia recuperando la senda de crecimiento y volver a una tasa de desempleo inferior al diez por ciento el gobierno de españa ha tomado iniciativas muy importantes para salvar miles de empresas y puestos de trabajo iniciativas que han hecho posible que millónes de trabajadores no hayan perdido su puesto de trabajo con los erte que un millón de autónomos cobren una prestación por cese de actividad y no tengan que pagar cortas

la mayor línea de avales y de financiación pública de este país los fondos a las comunidades autónomas

las medidas económicas y sociales aprobadas por el gobierno de españa han permitido construir un escudo social para proteger a los españoles y las españolas y por eso

a trabajadores temporales la aprobación del ingreso mínimo vital como nuevo derecho a configurar y consolidar el cuarto pilar del estado de bienestar las moratorias e hipotecas

la suspensión de desahucios la garantía de suministros entre otras medidas el gobierno de españa ha luchado desde el primer día contra la pandemia

económico y social habiendo defendido antes durante y después de la covid diecinueve la justicia social la igualdad de oportunidades la accesibilidad universal la ecología la transformación digital los derechos sociales y el feminismo nunca

como las adoptadas por el gobierno de españa y desde luego sin ellas las consecuencias de la crisis económica mucho mayores por eso las prioridades en esta reconstrucción social

de salud la protección de los más vulnerables en esta crisis y en

el gobierno de españa lo ha hecho además con diálogo social como eje en el que asentar las bases de reconstrucción del futuro y los socialistas vascos

a este diálogo social para proteger el tejido productivo y la actividad económica las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de este país nos están dando una lección participando en este diálogo social con ánimo constructivo de consenso también durante este año en euskadi hemos trabajado en la mesa de diálogo social con cinco grupos de trabajo de igualdad de género salud laboral

medidas urgentes ligadas directamente a la situación generada por la pandemia del covid diecinueve

repercusiones en materia de empleo y cohesión social dentro de este grupo de trabajo de empleo se alcanzó el acuerdo para completar las prestaciones públicas de las personas incluidas

anuales y se va a seguir trabajando en esta línea en el gobierno vasco

y esta necesidad ha sido plasmada dentro del acuerdo de gobierno entre el partido nacionalista y el partido socialista de una forma clara

del empleo la mejora de la calidad del mismo y la reactivación económica para superar los efectos negativos de la covid diecinueve y todo ello

social así la vicelehendakari idoia mendia ha destacado que el departamento de trabajo y empleo se va a guiar por tres conceptos trasversales

por otro lado buscar la innovación en la búsqueda de soluciones al empleo y el reforzamiento de la protección social y por último la igualdad de oportunidades de mujeres

del gobierno así se ha desarrollado el segundo paso dado tanto en españa como en euskadi un proyecto de país de transformación digital

la justicia social el empleo la ciencia y el apoyo a sectores estratégicos la iniciativa que hoy debatimos hace referencia a despidos masivos en empresas industriales en euskadi que se podrían producir en los próximos meses pero que

todavía no se han producido precisamente gracias a las medidas que se han adoptado para evitarlos y que se van a mantener y alargar el tiempo que se considere necesario es por ello por lo que la ministra de trabajo yolanda díaz está acordando dentro de la mesa de diálogo social

que hasta ahora se mantenía hasta finales de septiembre alargarlo hasta el dos mil veintiuno para esquivar estos despidos que pudieran producirse durante este otoño es lo que se ha venido llamando la prohibición del despido para proteger a los trabajadores frente a las circunstancias

en su día decretadas por el gobierno de españa este precepto recoge que no se pueden entender como justificadas la extinción de los contratos de trabajo ni del despido por causas relacionadas con la pandemia esto va a contener los posibles despidos

de cerca de las ochocientos doce mil quinientos personas que se encuentran en erte en estos momentos en toda españa

los despidos eso va en contra de la constitución pero sí se pueden encarecer esos despidos y eso es lo que se ha hecho con las medidas adoptadas

en la enmienda transaccional que se ha llegado a acordar al final entre

eh bildu aunque nosotros podemos compartir cosas porque evidentemente nosotros también nos solidarizamos con los trabajadores que puedan verse afectados por los despidos en los próximos meses y que hay que intentar conseguir que los efectos sean los menos lo menos negativos posibles como consecuencia del covid

sí que tenemos que respetar creemos que tenemos que respetar la autonomía de las partes a la hora de negociar

trabajadores en esa negociación porque el parlamento vasco no puede impedir que se realicen esos despidos no puede obligar a que no se realicen como tampoco puede obligar a que no puedan entrar en esas posibilidades de negociación

que las partes afectadas tienen puesta sobre la mesa conforme a la normativa vigente y tampoco estamos de acuerdo

transaccional porque aunque sí que evidentemente recoge esa solidaridad con los trabajadores etcétera etcétera

plasma en toda su enmienda a la totalidad es que la única solución a todos los problemas es que tengamos marco vasco de relaciones laborales que es lo que siempre ha venido planteando para todas las cuestiones y es la única solución que plantea al mismo y por eso nosotros lo que vamos a defender es nuestra enmienda a la totalidad

que apuesta precisamente por ese apoyo a los trabajadores pero también con el respeto a las reglas del juego

de la negociación que tienen las partes y también
apostando por el diálogo social amaitu mesedez como solución también mascarilla mascarilla

para empezar decía en euskera quisiéramos mostrar nuestra solidaridad con todos los trabajadores que sienten la amenaza del desempleo en hombros uno de los objetivos de este parlamento es hacer posible una economía fuerte pero también debe ser una economía justa el covid ha venido a incidir de una forma muy abrupta y simultáneamente prácticamente en todos los sectores todo el tejido

desde la automoción todo lo que tiene que ver con la máquina herramienta el comercio salvo alguna excepción como el comercio digital o algunas empresas de alimentación todos han sufrido

en su balance en estos últimos meses y el peor síntoma de un resfriado en la economía siempre los despidos

en las cotizaciones a la seguridad social que se han dado en euskadi desde el inicio de la crisis

a una tasa de desempleo por debajo del diez por ciento que habíamos alcanzado ya

del covid y para ello es importante la apuesta es continuar la transformación de la empresa vasca hacia los nuevos mercados que sigan generando valor añadido

lo que genera puestos de trabajo bien remunerados y en buenas condiciones y mantener

hasta que salgamos de nuevo de esta nueva crisis sí hace el gobierno y también hacemos nosotros un llamamiento explícito a los empresarios para que sigan invirtiendo para que no retraigan la inversión para que la recuperación siga siendo sea vigorosa tal y como se espera para el veintiuno y el veintidós

con las declaraciones que se han hecho desde el gobierno vasco lo que pasa que

confunden un poco porque da la sensación de que el gobierno ha hecho un llamamiento general a la rebaja a la moderación salarial y no es cierto yo acabo de explicar

en nuestra opinión cuál ha de ser la forma de diálogo en las empresas analizando

cuál es la situación y la coyuntura actual y haciendo una planificación a medio largo plazo eso es lo que se dice desde el gobierno vasco un llamamiento general a la moderación salarial esto no va de competir solo en sueldos eso lo sabemos de sobra pero es que aparte

una alternativa y durante la crisis del covid durante los meses peores del confinamiento hemos visto por su parte por la parte de eh bildu señor casanova que se han propuesto dos medidas principales que es

no esenciales hasta no sabemos cuándo yo le hago una pregunta en esta segunda oleada las seguimos cerrando o las mantenemos abiertas

y la segunda es retrasar las elecciones hasta sine die pero bueno hasta octubre que es el límite que marcaba la ley

celebrando este debate porque la cámara estaría disuelta es decir el peor escenario posible después hay un debate que para mí sí da

que es el tema de los despidos colectivos en empresas que han tenido beneficios muy recientemente y ahí

es muy interesante pero más allá de los discursos está la legislación laboral y creo que todos los que estamos presentes en este parlamento tenemos también presencia en el congreso

existirán causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas

un ere está aquí cómo auditamos cómo certificamos esas previsiones cómo las cuantificamos

en parte también en otros órganos que tienen en el congreso de los diputados que es el que tiene la competencia pero

buenos días nuevamente a todos nos cuesta nos cuesta mucho entender la postura en este caso del grupo podemos

han trabajado alguna vez en la vida han cotizado a la seguridad social

o han sido autónomos para entender todo esto la persona que les habla lleva treinta años a la espalda cotizados les puedo asegurar y tengo la experiencia de dirigir un negocio con empleados a mi cargo sin ningún tipo de subvención y ayuda créanme cuando les digo que este es un tema muy importante para la población es muy duro para un empresario que tiene que despedir por razones justas señor hernández ofrece un panorama para el futuro de nuestra tierra ciertamente estoy de acuerdo con usted en un tema en que van a venir meses muy duros lástima que sea lo único que compartimos de su discurso no compartimos más porque ustedes como suelen hacer confunden su ideología con la realidad ustedes sufren de falsa conciencia

bajo nuestro punto de vista no existe una lucha de clases tal y como ustedes la plantean empresarios y trabajadores es cierto que en ocasiones tienen intereses enfrentados que derivan en conflictos que son fruto de las relaciones del día a día laborales

ambos han de trabajar por la subsistencia de la empresa por la cuenta que les trae el modelo de lucha de clases que ustedes

pero ya los tiempos han cambiado mucho desde mil ochocientos cuarenta y ocho es obvio que el contexto actual

pero ustedes piden un imposible que es blindar los puestos de los trabajadores a costa de la empresa o lo que es aún peor a costa de las maltrechas cuentas públicas

en cualquier caso también es denunciable la incapacidad de pnv y de psoe en realidad respecto al empleo

prefieren esconder la cabeza y dar falsas esperanzas a los vascos

pero repito lo que más nos llama la atención es que no hemos visto ni un solo recorte nadie ha hablado de recortes repito ni solo un recorte

tenemos ahora dos vicelehendakaris seguimos teniendo chiringuitos ideológicos seguimos teniendo pública más cara por habitante de españa seguimos teniendo número de políticos más alto por habitante de europa y así podríamos seguir hasta mañana por eso les pido señores de podemos que renuncien al populismo barato y

sabemos que desde que se han convertido en casta política ustedes siguen trabajando junto a ellos pero seamos sinceros su iniciativa es inviable

empresarios y trabajadores que nos necesitan muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal talde popularra ciudadanos gil jauna zurea da hitza

muchas gracias señora presidenta la pandemia tiene consecuencias sanitarias económicas es obvio y

en que no estaríamos aquí hablando este tema si no fuese por la pandemia de verdad que

a votar en contra de esta proposición no de ley y lo lamento porque llegamos a este parlamento

de tender manos de hacer propuestas y en definitiva de ser útiles a los ciudadanos pero en esta ocasión no nos queda más remedio que votar en contra

regular su plantilla y ajustarla a las necesidades del mercado en momentos de crisis es un gran error

condenar a las empresas a la quiebra y a toda su plantilla al paro

en años anteriores para mantener los empleos que ahora o en el futuro no van a ser necesarios

sabe que sin beneficios simplemente no tenemos empresa no hay forma de mantener un proyecto empresarial si resulta que no es

a mantener temporalmente temporalmente solo sería posible empleos innecesarios es pan para hoy

y es pretender que esos beneficios sirvan para sustituir al sistema social de protección que ya tenemos establecido

y flexible y en este momento casi diríamos caótico porque estamos en una crisis inédita y de escala global cuya evolución en realidad nadie es capaz de predecir

y les impidiéramos adaptarse y recordemos que el coste salarial no se recorta porque tengamos o las empresas tengan una especial inquina hacia los trabajadores sino porque es el principal coste el que más afecta a los resultados si hiciéramos esto si obligáramos a mantener las empresas este tipo de coste rígido

todo el proyecto empresarial que a su vez es generador de riqueza y de empleo para muchas personas

estaríamos haciendo un entorno poco atractivo para otras empresas y por lo tanto menos competitivo

las empresas señores no despiden por capricho o por usura como se desprende de su enmienda a la que votaremos negativamente

a un empresario o un directivo que tener que desprenderse de equipos

a los que han formado durante años y en los que han invertido tiempo energía ilusión y dinero y con los que han compartido

cuando una empresa cuando un directivo siente la obligación de tener que acudir

es porque prudentemente no deben poner en peligro

y como sabe cualquier empresario de primero de empresa cualquier alumno perdón de primero de empresariales esto

una gestión responsable no tenemos ninguna duda de que cuando las empresas hacen esto es porque es el último recurso estamos seguros de que es así y estamos de acuerdo con ustedes en que cuando este periodo de colaboración se acaba

los empleados deben estar adecuadamente cubiertos por el sistema público que nos hemos dado de protección social me preocuparía que estos empleados no recibieran las indemnizaciones que marca la ley no estuvieran cubiertos por las prestaciones de desempleo establecidas

y reciclarse para acceder a otro puesto de trabajo quizás

hablaremos otro día y es que las empresas y los empresarios

el enemigo es la pobreza y el paro y las empresas son la solución que tengamos personas emprendedoras

dejarse la piel por levantar un proyecto empresarial generador de riqueza y de empleo

que deberíamos reconocer y fomentar en vez de atacar denostar criticar y dificultar y dicho esto y no es incompatible en absoluto manifestamos nuestro apoyo a todas las personas que debido a la crisis del covid

es una consecuencia de la epidemia no deseada por nadie pero que tenemos que afrontar de la manera más razonable posible y en segundo lugar votaremos que no porque entendemos que el papel del gobierno no es sostener con ayudas públicas

sino crear las condiciones para que las empresas vascas puedan crecer sanas y competir con éxito en los mercados internacionales no queremos

gracias a ayudas o contratos públicos arbitrarios que cada cual haga su papel el gobierno regula y facilita la actividad empresarial

y la que compite libremente en mercados internacionales que cada vez están más complicados

con la intervención del gobierno en las empresas privadas con los contratos las subvenciones y las tomas de participación

que generan clientelismo y a veces corrupción y en euskadi llevamos cuarenta años gobernados por los mismos y este fenómeno lo conocemos bien

aprovecho para anunciarles que nuestro compromiso con la regeneración política es firme y que investigaremos y denunciaremos todos los entramados clientelistas

las subvenciones dudosas los contratos cocinados que durante décadas han crecido en euskadi como hongos y lo vamos a hacer porque eso es lo que esperan de nosotros los miles de ciudadanos vascos que nos han votado

porque se sienten desencantados con el sistema político actual estamos

es para renovar las viejas políticas cada día engañan a menos gente

y escuchar los ciudadanos vascos nos están diciendo que quieren una administración limpia y eficaz que no esté al servicio de ningún proyecto político

sino que trabajaremos activamente por la regeneración política de este país y en esta tarea nos encontrarán con la mano tendida todos los partidos instituciones asociaciones y grupos
que de verdad se sientan comprometidos con este objetivo muchas gracias eskerrik asko

se equivoca señor gil al decir que si no fuera por la pandemia pues no estaríamos hoy ante una

se lo digo sinceramente porque en la anterior legislatura y seguramente en otras

porque en este caso como he dicho antes en mi intervención sobre la cuestión que traemos a la cámara la excusa que están utilizando algunas empresas para hacer esas prácticas es la situación creada tras la pandemia pero en otras ocasiones ha sido la situación por la anterior crisis o simplemente por contextos relacionados con sectores concretos etcétera pero sí tiene usted razón en una cosa hay un componente ideológico en nuestra iniciativa desde luego hay componente ideológico

pero creo que en prácticamente todas las iniciativas que nosotros podamos traer a esta cámara y no nos engañemos hay componente ideológico en la mayoría de las iniciativas que cualquier grupo traiga a esta cámara y hay componente ideológico

tema que debatamos en esta cámara es verdad que sobre algunos temas más que en otros y yo sabía que se nos iba a decir porque se nos ha dicho muchas veces

las medidas que se han adoptado desde el gobierno del estado son un dique de contención muy importante pero precisamente por eso no es aceptable

que han tenido beneficios millónarios en los últimos años que son empresas importantes que no van a desaparecer

y que encima han tenido respaldo de lo público con dinero público

se pagan con dinero público suponen un ahorro

económico a las empresas muy importante por eso décimos que no es aceptable que hagan ese tipo de planteamientos nosotros no le estamos pidiendo al gobierno vasco que prohíba los despidos o que haga cosas que no puede hacer estamos pidiendo que tenga y a este parlamento

que tenga una actitud contundente para decir que determinados planteamientos que hacen determinadas empresas empresas potentes

son planteamientos que no son aceptables porque no es aceptable y así lo pensamos que empresas que han tenido importantes beneficios que no tienen problemas reales les digan a los trabajadores que hay que recortar salarios o hay que reducir plantillas no se trata de mantener puestos de trabajo que no sirvan para nada se trata de mantener puestos de trabajo que sirvan para que esas empresas puedan seguir adelante o es que las empresas solo pueden tener futuro

luego décimos que no hay lucha de clases yo creo que en estos asuntos es evidente que hay lucha de clases por eso nosotros

pero que nos parece fundamental para que las y los trabajadores en estas empresas sientan el respaldo de las autoridades públicas el respaldo de la administración pública el respaldo de la cámara que representa la soberanía popular y una segunda para pedirle como decía antes al gobierno vasco que tiene que tener otro papel en la intervención

esos intereses de esas empresas y eso tiene efectos

y eso es lo que nosotros le pedimos termino ya porque voy a estar dentro del tiempo señora presidenta pero sí quería decirle algo a la señora martínez mire

yo toda mi vida llevo haciendo lo mismo que hizo mi madre mi difunto padre mi abuela mi abuelo mi otra abuela y mi otro abuelo

también en mi grupo parlamentario yo les conozco y han trabajado y algunos han trabajado en la administración pública otros han trabajado en empresas privadas yo he trabajado en la empresa privada y he tenido unos estudios porque mi madre y mi padre que no tuvieron estudios trabajaron

más que muy poco por la discriminación que sufre la mujer por favor no nos acuse de ese tipo de cuestiones
porque si de algo estamos orgullosos es de ser clase trabajadora existe clase trabajadora y existe la lucha de clases y usted lo ha mostrado hoy aquí eskerrik asko

o por ejemplo de estados unidos lo que nos viene a la cabeza son esas fronteras rectas trazadas

cuando una empresa dice que tiene que despedir justo al quince por ciento de los trabajadores

de la plantilla lo que está haciendo son recortes no ligados a un bajón en la actividad productiva sino un plan predeterminado para recortar un número de la plantilla son recortes a escuadra y cartabón

ni por usura yo estoy medio de acuerdo por capricho no

de las personas incluso a costa de la oportunidad de las personas

los mercados adoran los recortes de plantilla y cuando ciertos directivos de empresas llevados por esa lógica de tiburones empresariales lo único que tienen que ofrecer es un mayor dividiendo o un mayor de valor de la acción a sus accionistas

para provocar eso por usura y sí está pasando y parece mentira que aquí desde la izquierda tengamos que explicar cómo funciona el mundo

a aquellos que se presumen tan cercanos a ese mundo porque también hay empresas que echan a parte de la plantilla con más antigüedad

laboral mayor y lo sustituyen o bien por gente nueva para establecer dobles escalas salariales o bien para subcontratar el trabajo a una subcontrata en unas condiciones laborales pues muchas veces ínfimas y ahí tenemos el corolario por ejemplo de accidentes laborales aparte de precariedad e inestabilidad sí eso pasa en el mundo de la empresa y no se trata de satanizar ni de decir que todo lo que hacen los empresarios las empresas está mal ni mucho menos

entre empresa empresario asociación empresarial

cabe aplicar uno u otro sujeto y en este caso sí que décimos que las empresas que tienen beneficios tienen una responsabilidad para con su comunidad y yo no voy a imitar

las virtudes de la constitución española pero es que la función social de la propiedad está incluso consagrada en esa propia constitución y lo que no se puede es llenarse los bolsillos

y a primeras de cambio plantear los despidos como única solución

hitz egin behar dela eta hor sortzen da adibidez eufemismo bat esatea ajustes no traumáticos o salidas negociadas salidas pactadas

menos trabajadores o se quedan todos con menor coste de la empresa saiatzen ari dena da egiten orain datozkizue

kaleratzeak ez egotea y no podemos permitirnos tener una consejera que ejerce

ideológico de la patronal para imponer un debate de forma forzada que no se está dando en ningún otro lugar de europa occidental

está poniendo en estos momentos encima de la mesa la cuestión de la bajada de los salarios

es una consejera una consejería y un gobierno que creo que si algo domina es el control de los medios de comunicación

oportunidades de aparecer en medios de comunicación específicamente o especialmente los públicos también en los demás para rectificar corregir o matizar ojalá

señor hernández yo creo que evidentemente la preocupación porque se mantengan el mayor número de empleos de que se mantenga el mayor número empresas porque manteniéndose el mayor número de empresas vamos a conseguir mantener también el mayor número de empleos lo tenemos absolutamente todos y nosotros también en mi intervención he defendido y también está recogido

en el acuerdo de gobierno nosotros vamos a apostar por el diálogo social porque evidentemente entre todas estas medidas que vamos a tener que seguir

que el diálogo con los trabajadores con la representación de los trabajadores la representación de las empresas y el propio gobierno vasco es lo fundamental

las medidas más adecuadas para conseguir que esos efectos negativos que están sufriendo las empresas en los trabajadores sean los menos posibles y en eso estamos y en eso nos van a encontrar al gobierno vasco lógicamente como no podía ser de otra forma eso se lo garantizo señor hernandez y por tanto nosotros vamos a seguir apoyando

y el mayor mantenimiento de puestos de trabajo dentro de nuestra comunidad autónoma y por tanto esa preocupación la tenemos

la menor duda y ahí nos vamos a encontrar siempre en buscar las mejores soluciones para conseguir los mejores resultados para todas nuestras empresas

iniciativa no hemos conseguido llegar a un acuerdo pero no hemos conseguido llegar a un acuerdo se lo he explicado yo perfectamente en mi primera intervención y es porque creo que

que se tiene que impedir los despidos por parte del gobierno vasco hacia las empresas o que se tienen que eliminar dentro del ámbito de la negociación colectiva determinadas posibilidades que tienen las partes y evidentemente

las partes son libres de decidir evaluar porque dentro de las empresas nadie mejor que esa empresa y sus trabajadores y sus representantes

que pueden buscar para poder seguir todos juntos adelante porque se trata de seguir todos juntos en las mejores condiciones posibles para que los efectos sean los menos

que estamos sufriendo como consecuencia de esta pandemia y que todavía nos queda tiempo y por tanto tenemos que recorrer un camino y ese camino

cogidos de la mano todos si podemos y llegando a acuerdos todos entre todos los grupos políticos eso por supuesto yo estoy de acuerdo y también

seguiremos viendo las caras aquí en otras iniciativas seguro que llegaremos a acuerdos en muchos casos nosotros voluntad de acuerdo tenemos pero le he explicado porqué en las razones que yo no veía porque esta iniciativa no estaba bien

en el fondo ya le he dicho que evidentemente cómo no vamos a estar de acuerdo en que lo mejor es buscar las mejores medidas para que se mantenga el mayor número de empresas

comunidad autónoma ahí nos va a encontrar y en el acuerdo de gobierno desde luego está muy claro todas las medidas que se han recogido para conseguir ese objetivo y por tanto nosotros vamos a apoyar nuestra enmienda a la totalidad que recoge más claramente ese apoyo a esas medidas

importante en el camino que tenemos que recorrer a partir de ahora para conseguir esa reconstrucción social nada más y muchas gracias eskerrik asko

bai eskerrik asko señor gil yo comenzaré diciéndole que nadie puede alzarse en portavoz de los abstencionistas

que tampoco se puede arrogar como portavoz de la mayoría cuando la sociedad le otorga en este parlamento un papel de momento no mayoritario en segundo lugar le diría ha hablado usted de chiringuitos y demás de instituciones

las instituciones vascas estándares de transparencia homologados internacionalmente son bastante más altos que la mayor parte de las instituciones

y en tercer punto también ha mencionado usted la palabra corrupción la corrupción percibida y real demostrada en nuestra comunidad es bastante más baja también que en muchas de sus comunidades por tanto

al señor hernández le quiero recordar que la ministra de trabajo es de su partido eh quiero decir en euskadi

gran cantidad de miles de millónes de euros de ayudas a fondo perdido y en crédito por parte de la unión europea

una cartera potente de proyectos a presentar ya veremos a españa

en qué estado le cojan esperemos que muy bien y al señor casanova dice usted que se impone que la consejera es un rompehielo ideológico que impone el debate de los salarios cuando el tema no está encima de la mesa en europa bueno en primer lugar obviamente está encima de la mesa constantemente

es un aspecto que tensiona la sociedad todas las sociedades del mundo lo que ocurre es que bueno es posible que aquí esté un poquito más en plaza publikoan gehiago

nosotros vamos a volver a verbalizar por si no queda claro que el gobierno no hace un llamamiento general a la rebaja de los sueldos

y sí la rebaja de sueldos puede ser una solución a veces sugeridos por el propio comité de empresa que en solidaridad a los compañeros que pudieran ser despedidos bueno optan por rebajarse el sueldo o rebajarse

voy a terminar con una metáfora que es una metáfora falsa es un bulo eso de que en japón la crisis es sinónimo de oportunidad la crisistunidad que decía es falso pero

para irudikatzeko apur bat esan nahi dudana los erte han sumido a las empresas en un estado de hibernación del cual vamos a ir saliendo por suerte parece que

menos y con un poder adquisitivo a la fuerza algo mermado pero yo creo que sí hay motivos para

productiva muy sólida que ha sabido reinventarse en todas las crisis anteriores y también

en segundo lugar porque el enfoque de la ue ya no es de austeridad por austeridad ahora se opta más por políticas anticíclicas por orientar la producción hacia sectores de futuro y en tercer lugar porque euskadi trabaja ya en una cuarta revolución industrial está trabajando no va a llegar como la toma de la bastilla no es una revolución que vaya a hacerse como la toma de la bastilla en una sola tarde

de todas las variables que tienen que ver con esta revolución ya se están dando ya se está trabajando en ello por tanto badago

que la pandemia que la crisis anterior son excusas

no son realidades bueno pero aclarémonos por favor tubacex

son un problema o son una riqueza desde nuestro punto de vista está claro que su presencia en euskadi

riqueza y empleo y nos gustaría que hubiese muchas más empresas de este tipo y de otros tamaños y de otros tipos y de otros sectores por lo tanto creo que lo que no procede de ninguna manera es que nos dediquemos a insultarles llamándoles empresaurios usureros chantajistas etcétera sí que estamos de acuerdo en que

para conseguir que vengan muchas más empresas de este tipo

es una estrategia clara una estrategia bien definida que nos permita a partir de ahí poner todos los medios públicos al servicio de esa estrategia una estrategia para ayudar a las empresas

todo el mundo tenga más riqueza para que se paguen más impuestos para que haya más dinero público también para que se pueda repartir más dinero primero antes de repartir hay que generarlo en ese sentido nada una ecuación sencilla eh primero pensar la estrategia consensuarla apostar

porque efectivamente pensamos que todos compartimos un objetivo supongo y es que queremos que la red empresarial de euskadi se incremente que venga que esto sea un territorio más atractivo para más empresas que haya más gente

en vez de pedir empleo ofrecérselo a otros y que en ese sentido tengamos una sociedad mucho más rica y mucho más próspera

bai no se ha hecho la llamada a votación y tenemos

gracias señora presidenta bien desde el grupo popular ciudadanos entendemos oportuna esta iniciativa en el primer pleno

hemos tratado el primer punto el segundo punto del orden del día una iniciativa la proposición de ley de reforma parcial del reglamento y también

como explicaré brevemente hemos conseguido un acuerdo con los grupos enmendantes así que yo creo que la disposición es de trabajar en la cámara en relación con

explicarla brevemente es necesario de verdad y eso lo hemos visto todos y los que tenemos andadura parlamentaria hemos visto que es necesario un análisis completo

un análisis que podemos hacerlo de diferentes maneras los servicios jurídicos podrán hacer su informe sin duda alguna de la de la misma manera que han contemplado deficiencias o insuficiencias en relación con el voto telemático el voto delegado las sesiones

van a contemplar en muchas otras cuestiones que afectan a la actividad parlamentaria a la organización parlamentaria al control al impulso a las comisiones de investigación es decir hay una serie de cuestiones y muchos aspectos que

y después también un análisis y unas propuestas de los propios grupos parlamentarios

en la última reforma se fue bastante digamos voluntarista en algunas cuestiones y ello ha producido que el propio reglamento se haya incumplido en algunas cuestiones o no haya respondido a una

aceptable correcta utilización y aplicación y eso

en el parlamento vasco al terminar la octava legislatura se procedido a la aprobación de un nuevo reglamento que no satisfizo a todos los grupos ya que bueno dejó fuera

sin duda que contribuirían a mejorar el trabajo de impulso legislativo control del gobierno que

fuera algunas cuestiones bueno se aprobó lo que se aprobó pero algunas cuestiones quedaron fuera

en la disposición adicional segunda del reglamento de la cámara y el treinta de julio del dos mil once se aprobó una primera modificación del mismo previo informe o dictamen elaborado en la

adoptó un acuerdo en relación con que se daba en el plazo de un mes desde la aprobación de la iniciativa se proceda a la constitución en el seno de la comisión de reglamento de la ponencia prevista y después los trabajos a desarrollar por la ponencia y se iniciarán a la mayor brevedad posible con el fin

sobre la aplicación del reglamento así como las modificaciones que se estimen necesarias bueno

terminó sin resultado alguno igualmente en sesión celebrada el nueve de marzo de dos mil diecisiete el pleno de la cámara aprobó una enmienda de transacción

con el mismo o similar tenor literal en relación con que el pleno del parlamento vasco daba también ese plazo de un mes para la constitución de la ponencia teniendo en cuenta

también se fue incapaz de liderar ese proceso de reforma del reglamento constituida la ponencia la legislatura pasada igualmente concluyó legislatura once sin haberse elaborado informe de ponencia alguno ni consecuentemente reforma alguna de reglamento es decir es que quedan pendientes

muchas cuestiones para agilizar el trabajo parlamentario para adecuarlo a esas necesidades de información de transparencia de participación pero también de impulso y de control de la acción del gobierno más eficaz y en ese sentido pues tenemos que hacer algo

recordar que el apartado uno de la disposición adicional segunda del reglamento de la cámara dispone algo que no se ha cumplido dispone

y gobierno elaborará a esta un informe anual sobre la aplicación

ya ha estado bastante pendiente no se ha llevado a cabo ningún informe

nuestra actividad y además una vez constituida la ponencia así que

ya demuestra que tiene que ser corregida que tiene que ser modificada o que tiene que ser explicada para que el reglamento se pueda aplicar concretamente se han identificado y se siguen identificando diversas cuestiones y materias que necesitan ser perfeccionadas mejoradas e incluso reguladas ex novo por no venir contempladas en el reglamento bueno hemos tenido ejemplos esta misma mañana pero hay más cuestiones la actuación de la mesa de la diputación permanente en el pasado periodo de interlegislaturas

de iniciativas o con la actuación de la mesa en un periodo tan complicado

cuando estas se prorrogan en el tiempo por circunstancias excepcionales y o de crisis

en ese momento un papel que ha sido sufrido serias restricciones que eso nunca más se puede volver a

hay muchas más cuestiones que modificar sobre las garantías de un efectivo control e impulso de la acción del gobierno por parte de los parlamentarios miembros de la diputación permanente también aparte de la diputación permanente del trabajo ordinario hay muchas cosas identificadas la regulación de determinadas cuestiones de procedimiento que el vigente reglamento omite

otras cuestiones relacionadas con designaciones cuestiones que tienen que ver con las comisiones especiales es decir con tiempos con plazos es decir hay cuestiones importantes sobre las que trabajar parece muy necesario que se constituya una ponencia para que desarrolle muchos trabajos

y sobre todo para no defraudar para evitar habíamos puesto un plazo pero bueno hemos entendido que lo que hay que hacer es trabajar

con convicción y porque si no una vez más es decir si no hay reformas si no hay adecuación a esas necesidades de transparencia de participación de control del gobierno

sería lamentable que esa ponencia vuelva a resultar después de legislaturas nuevamente fallida o nuevamente eficaz por eso hemos presentado esa proposición no de ley al final hemos podido acordar con los dos grupos

entendido un plazo en dos mil veintiuno nos han pedido que

se ponga el plazo pues para poder trabajar bien pues lo asumimos en

pero vuelvo a decir no se puede volver a frustrar las necesidades de reforma de un reglamento porque

más agilidad supone un control más eficaz del gobierno una labor de impulso y un trabajo parlamentario que desde luego el beneficiario aparte

sí gracias presidenta egun on berriro compartiendo prácticamente la exposición que ha hecho el señor barrio agradecerle de antemano su disposición

con los grupos enmendantes esa enmienda transada que creo que se aprobará con amplísima mayoría en marzo de dos mil diecisiete tuvimos ocasión de debatir

una enmienda que fue aprobada por unanimidad y que es prácticamente igual a la propuesta que nos ha traído

ciudadanos en aquel entonces en mi intervención en el debate puse en evidencia que la reforma más importante más sustancial se produjo en dos mil ocho

a aquella modificación fue el principio del máximo acuerdo posible lo más importante de la modificación reglamentaria no fue tanto su alcance como lograr el máximo consenso en sus términos y hoy partimos de un hecho inédito que ha precedido el debate de esta iniciativa que ha sido la aprobación

vasco de forma urgente y por el procedimiento de lectura única ante la situación de excepcionalidad que ha provocado la persistencia de la pandemia del covid diecinueve y con el fin de garantizar el principio de representación tanto por ser eje del sistema democrático como por ser indispensable al funcionamiento

a las necesidades urgentes nacidas de la actual crisis la modificación reglamentaria de dos mil ocho permitió al parlamento vasco sin duda ser más ágil en su funcionamiento estar mucho más cerca de los intereses y de las preocupaciones de la ciudadanía y avanzar también con mayor transparencia

revitalizar el trabajo parlamentario y establecer mecanismos más eficaces para el control a la gestión del gobierno en dos mil once ya lo decía el señor barrio se realizó una modificación puntual y no sustancial de algunos aspectos del reglamento que algunos consideraron como ajustes y que se hacían necesarios por las disfunciones

el reglamento y sus modificaciones han permitido a la cámara ganar en credibilidad ante la sociedad y facilitar el trabajo parlamentario y aunque en ocasiones

a propuesta de los socialistas vascos el parlamento abrió un portal de transparencia porque hubo voluntad política para ello en el asunto que ahora nos ocupa lo que corresponde es dar cumplimiento a la

los socialistas vascos consideramos que las leyes y normas de funcionamiento como el reglamento del parlamento vasco deben ser normas y leyes sostenidas y más cuando su aprobación ha contado con amplísimos consensos lo que no es para nada incompatible con la incorporación de algunas soluciones a disfunciones

por eso el mecanismo que permite la disposición adicional segunda del reglamento para hacer revisiones ágiles de forma anual que lo vayan adaptando y mejorando

es un mecanismo que nos permite a esta institución como decía ser más ágil

ser más transparente y ser más participativa estoy de acuerdo con el señor barrio esperemos que en esta ocasión
el intento gracias eskerrik asko corcuera andrea

del año dos mil ocho ya modificado en el año dos mil once es todavía una ley joven

sobre todo en los reglamentos de los parlamentos es incluso dieciocho años más joven como institución parlamentaria que el propio señor barrio o el señor egibar en este parlamento por lo tanto estamos ante un joven del parlamento

soy posterior al reglamento del dos mil ocho es verdad es verdad que con el día a día se van detectando necesidades de adaptación necesidades de pequeñas modificaciones lo que pasa es que cuando se abre el melón de

básicas fundamentales en un parlamento pues las necesidades los deseos las voluntades de unos y de otros son en la mayoría de las ocasiones muy contrapuestas y si partimos de la base de que un reglamento requiere o es positivo que un reglamento concite la mayoría más amplia posible pues sucede

llevan aparejado el que nos pasemos años sin poder hacer

el grupo socialista y nosotros que luego ha sido transada aceptada por el señor barrio y transada

su disposición pretendía eso mismo hacer más realista la proposición no de ley porque conocemos la experiencia vivida porque sabemos lo que supone hacer frente a la reforma de un reglamento y porque poner unos plazos que

nosotros no es que estemos marcando un plazo a un tercero para que haga algo nosotros nos estamos autoponiendo un plazo que ya en otras ocasiones hemos incumplido porque somos conscientes de las dificultades que tiene el cumplimiento porque básicamente el cumplimiento del plazo o el que esta

de la disposición y de las posibilidades de acuerdo que haya en este sentido la enmienda que hemos presentado el grupo socialista y nosotros más que

de una manera positiva con la voluntad que lo presentamos más que la defensa de los intereses de la mayoría del gobierno es una garantía

para la minoría del parlamento para los grupos de la oposición porque el partido socialista y

en la cámara por lo tanto si se tratase de cumplir el plazo establecido de finales

haría falta más que poner en marcha el sistema de votaciones votos a favor votos en contra abstenciones

no se trata de eso porque estamos como decía intentando modificar

que regula nuestras relaciones y que tiene que ser como decía por supuesto expresión de la voluntad mayoritaria de la cámara pero también garantía para la minoría para los grupos minoritarios o para la minoría de la cámara yo creo que y ahí les voy a adelantar una creo que ya

parte de la posición en la ponencia creo que lo primero que tendríamos que eliminar es la disposición adicional segunda del reglamento

las leyes en general se hacen con una vocación de permanencia en el tiempo uno no va aprobando leyes para ir cambiándolas

en el estado español pero vamos lo demás lo normal no es que legislatura a legislatura vayan según el régimen de mayorías y minorías cambiando la legislación tiene una vocación de permanencia

cuando sabe lo difícil que es conseguir acuerdos mayoritarios pues me parece que es

no sé no sé por qué pepe rubalcaba y rodolfo ares a quienes tengo gran respeto

y si lo quitamos nos haremos un favor a todos porque

el propio reglamento ya establece posibilidades de adecuarse a los tiempos de modificarse a través de resoluciones interpretativas de la presidencia y otras instituciones parlamentarias que hemos venido practicando y que

por eficacia y para favorecer la seguridad jurídica por razón democrática también y para favorecer la participación ciudadana

una ponencia para el estudio de la reforma del reglamento del parlamento vasco en la comisión de reglamento y de gobierno e intento explicar estas razones eficacia

creo que la experiencia de los últimos meses en un contexto de emergencia sanitaria sin precedentes y con el parlamento vasco disuelto por la convocatoria electoral ha puesto de manifiesto la carencia de mecanismos parlamentarios adecuados para hacer frente a situaciones excepcionales y ahí entre otras cosas también la reforma que se ha propuesto en el primer punto del orden del día de esta

el reconocimiento de que el poder también el poder está sometido a las reglas jurídicas y trasladado a las reglas

un reglamento parlamentario implica reducir el margen de arbitrariedad del más fuerte y favorecer el principio democrático y el pluralismo político

véase la paradoja una ciudadanía activa participativa que ve

personas respectivamente decaen en manos de una institución que teóricamente les representa dar cauce a estos debates

ekimen herritar legegiletik datozen ekimenak dira no podemos seguir amparándonos en el reglamento de esta cámara para obstaculizar las iniciativas ciudadanas ni hacer alarde de ello no estamos entendiendo bien

si no somos capaces de apreciar el potencial que la sociedad nos ofrece estamos renunciando a valores democráticos que la participación ciudadana encarna y

nos negamos a cambiar que nos resistimos que nos cuesta cambiar

un mayor protagonismo y voz a la ciudadanía entonces

materiales y políticos a los que se enfrenta por ejemplo una iniciativa legislativa popular tenemos que demostrar que todo ese trabajo y ese esfuerzo que acompaña a la elaboración

que el trabajo de consenso de diálogo que lleva a cabo la ciudadanía la movilización todo este trabajo merece la pena porque luego merece la pena porque luego se verá

en que su propuesta será cuando menos debatida en esta casa seamos valientes además

incorporar otros mecanismos que están ya en marcha en otros organismos parlamentarios como son por ejemplo las mociones ciudadanas o la creación de una comisión de peticiones ciudadanas

a nuestro alrededor aprendamos de estas experiencias de otros lugares y abramos cauces

en este pleno exploremos fórmulas del parlamento abierto como el celebrado por cierto en navarra en torno a la soberanía alimentaria posibilitemos también que las competencias adecuadas y conocimientos sobre las

tic necesarias para determinadas herramientas

creadas en definitiva la ponencia es una buena oportunidad para valorar todas estas cuestiones a las que estoy haciendo referencia la ponencia y su informe deberían ser un buen punto de partida para construir acuerdos que nutran también

la anunciada ley de transparencia y de participación ciudadana de nuestra comunidad autónoma veremos si dicha iniciativa legislativa

empecemos a trabajar de forma conjunta en esta ponencia sobre cómo mejorar la participación de la ciudadanía

hace usted mención a diversas cuestiones y materias que deben ser

por no recogerse en el reglamento menciona también otras cuestiones que se han resuelto en el segundo punto del orden del día ya creemos como es la cuestión

alusión especial a las competencias de la diputación permanente cuando sus funciones se prolongan en el tiempo por circunstancias excepcionales como he visto como hemos visto creo que hemos tenido la diputación

historia si no estoy equivocada en la historia del parlamento y además ha sido realmente activa y usted conoce también como nosotras la cantidad de problemas que han surgido durante esta pandemia con el parlamento ya disuelto en el seno de esa diputación permanente

como así lo hemos demostrado y además denunciado en más de una ocasión

volvería otra vez a detenerme en los intentos que ha habido para la modificación de este reglamento han sido tres solamente ha habido dos

de participación política por ayudarnos en nuestra labor de impulso y control al gobierno lo he dicho también en el punto anterior atendiendo eso sí a los criterios de

de la ciudadanía no en definitiva debería de regular nuestra labor pero también facilitarla

momentu egokiena ekimen hau aurkezteko errespetu osoz esan dudan moduan y es que los grupos que sostienen al gobierno se preocupan y ocupan precisamente de eso

al gobierno por eso creemos que una modificación reglamentaria en esta legislatura no va a atender a las necesidades que tanto usted como otros grupos y nosotras tenemos en mente

que se ha aplicado en nombramientos y las pocas votaciones que hemos visto hasta ahora pues creo que hoy sí voy a estar en lo cierto y ojalá me equivoque

que en las que instamos al gobierno hacer ciertas cosas y luego cumple o no estamos hablando de algo mucho más serio

que nos dirige y también nos ampara esta modificación por tanto nos puede dar alas o nos las puede cortar modificación que

correlación de fuerzas diferentes que se pongan de acuerdo para hacer los cambios que entonces consideren legegintzaldiaren hasieran gaude

que escucharemos o si no lo haremos en privado pues que estamos equivocadas

como decían en el punto anterior pues que cuando los contenidos son sensatos hay acuerdos el señor iturrate también hablaba de acuerdos amplios lo ha dicho en varias ocasiones

que les da la mayoría absoluta y se quedan precisamente

veremos si verdaderamente se va a actuar de acuerdo a los principios democráticos si es así pues ustedes van a tener cuatro años para recordármelo y si estoy equivocada igual que en el año dos mil diecisiete ya me lo dirán

para repetirles lo que a día de hoy pues tenemos más que claro que vamos a volver a ver el rodillo besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea

tenemos cuatro años en teoría por delante pues para trabajar sobre un tema que está pendiente

y yo lo que confío es que seamos capaces de superar el rodillo seamos capaces los grupos de la oposición

y supongo que los grupos que están hoy en el gobierno también tendrán visión de que en algún momento puedan estar en la oposición y puedan beneficiarse de una agilidad en relación con el trabajo de esta cámara así que yo creo que si hay visión parlamentaria dentro de los grupos que apoyan al gobierno dentro del partido socialista o dentro del partido nacionalista vasco pues verán que el reglamento tiene que ser

un instrumento al servicio de la democracia y de la actividad parlamentaria desde luego en cada momento y en ese sentido

y confiemos en que eso sea así yo también decirle al señor iturrate que ha hecho dos menciones como esta iniciativa como un clásico

el turrón el almendro vuelve por navidad las películas de ben hur y la película de la túnica sagrada también vuelve por semana santa bueno esperemos que esto no sea la pasión según san mateo y que no vuelva por navidad carbón o sea que es lo que

la sociedad si no somos capaces de llegar a un acuerdo en algo que está pendiente también quiero decir que

o sea un elemento fundamental para justificar su modificación pero también tenemos que decir que hay parlamentos donde el reglamento se modifica todos los años en relación con las necesidades como es el parlamento europeo o sea que en ese sentido pues

diferentes pero tampoco hay que tener miedo a esa cuestión si se necesita

y para finalizar yo también me despido yo también me despido de la señora berriozabal me acabo de enterar de que nos abandona

del gobierno seguramente y en cualquier caso pues yo le deseo

hemos tenido muchas confrontaciones y muchas diferencias pero nos ha unido una causa

como dos hermanos muchas gracias eskerrik asko

euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza sí con permiso de la presidencia desde el escaño tan solo
para hacer una puntualización en primer lugar he dicho que espero

esta posible modificación del reglamento no sea una posibilidad frustrada los socialistas vascos nos hemos comprometido a trabajar en ello pero sí me gustaría

blanco ella habla de rodillos ha habido toda una legislatura la anterior en la cual el gobierno en minoría muchas de las iniciativas que la oposición ha querido sacar adelante se ha unido para hacer esas modificaciones podía haberlo hecho con la modificación

andrea simplemente para comentarle a la representante del pse bueno decía por qué no por qué no nos hemos puesto de acuerdo en la legislatura pasada

legislatura que el no acuerdo de la legislatura pasada por todo lo que he dicho en mi primera intervención y yo entiendo que la seña gorrotxategi tenga confianza en este acuerdo en la creación de esta ponencia porque es nueva

estos años y unos meses atrás lo que me sorprende es que el señor barrio esté tan confiado en esta ponencia creo que aquí solamente pueden pasar dos cosas una o que no se llegue a nada y el año que viene tengamos otra vez señor iturrate

realmente sea un acuerdo bueno con esa amplia mayoría que significa solamente la mayoría absoluta tenemos cuatro años para hablar tenemos cuatro años para
ver qué es lo que ocurre besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

gainetik dagoelako podemos decir que claramente

la exigencia del euskara tanto en la valoración como mérito

y en la asignación de los diferentes perfiles lingüísticos en las plazas

convocatorias públicas no es simple plus sino que es un elemento absolutamente determinante a la hora de acceder a un empleo en la administración esta situación a nadie se le escapa que ha generado un claro malestar en los aspirantes o a personas que ya están en la administración

la propia administración pública porque ven que obviamente sus posibilidades se ven mermadas respecto a aquellos aspirantes

con la exigencia excesiva exigencia del euskera en relación a otros méritos o que tienen que acreditar un perfil que no pueden

dugunean y que desde luego hay que buscar un equilibrio en lo que

el euskera una de las lenguas oficiales en nuestra comunidad autónoma con la exigencia del euskera en las ofertas públicas de empleo y sobre todo también

a una persona que está trabajando en la administración pública el mismo nivel de euskera

de prestar un servicio en el goierri donde hay una alta demanda de hablar en euskera y de prestar un servicio

el euskera no se habla y la relación con la administración prácticamente

en el caso de vitoria nosotros consideramos

públicas es necesario y es hora de corregir una injusticia que se ha perpetuado

ver mermadas sus aspiraciones a la hora de acceder a un empleo público como decía no puede primarse ezin diogu lehentasunari eman euskarari

y tampoco podemos dejar como sucede en el ámbito sanitario que muchos profesionales se marchen por no saber

exigido luego quiero hacer referencia a otra de las cuestiones que siempre he puesto

la primera vez llevo catorce años de parlamentaria y los parlamentarios que llevan tiempo en esta cámara

del partido socialista y otros que obviamente

esta iniciativa en la cámara como decía por una razón de convicción y de justicia y más además cuando tengo la suerte de conocer y de hablar

de elección quiero que el resto de los ciudadanos también puedan elegir cuando hablan euskera o cuando hablan castellano o cuando hablan una de ellas

a la administración en castellano sin ningún tipo de problema como decía se producen disfunciones yo creo que es una gran disfunción como decía

sepan euskera cuando la demanda en euskera es bastante pequeña en relación a la que pueda ser en otras zonas del país vasco

esta yo creo que también es palpable también como decía la he señalado en muchas de mis intervenciones

la exigencia del euskera desproporcionada como decía en relación a otros méritos como la formación o la experiencia el acreditar un determinado

como mérito lleva a que en las listas de contratación y esto es muy

en las especialidades médicas y en las especialidades sanitarias pues los profesionales gracias a esa valoración del euskera que a un pe ele dos se valora

o de un master pues lleve a que las personas que puedan acreditar ese nivel de euskera se les dé esos dieciocho puntos pasan a los primeros puestos de la lista

no es la demanda que puede estar en otras zonas en otras zonas como la zona del goierri

sí hay una demanda de atención en euskera y las plazas que están perfiladas están sin cubrir porque los sanitarios que pueden elegir no van a esas

se lo he dicho al lehendakari que también lamento que no pueda estar ahora en este debate pero creo que hay que darle una vuelta ya a la política lingüística y creo que además flaco favor le hace ez dio mesederik azkenean euskarari egiten zeren azkenean

duelako en este sentido como decía vuelvo a presentar esta iniciativa en la que pedimos cuestiones ya reiteradas

que no se priorice el conocimiento del euskera sobre la formación

como a la revisión de la puntuación exigida del euskera como mérito y que se respete

y por otra parte creemos que es necesario garantizar el principio de acceso

en la provisión de puestos de trabajo que es un principio constitucional por tanto un derecho de todos los ciudadanos recogido en el artículo veintitrés de la constitución no tengo más que una enmienda

la enmienda del partido socialista y del partido nacionalista vasco pues poco dice no se viene a decir que se siga

yo en este punto sí que lamento y quiero hacer mención expresa y además

quiero recordar y todos recordaremos la campaña de la señora mendia en las elecciones del dos mil dieciséis haciendo referencia a lo discriminatorio que era la política lingüística

a un empleo en la administración pública incluso sacaron un vídeo no sé si era porque aquello era en campaña electoral pero también

a la hemeroteca la propuesta que yo hoy presento aquí

exactamente el partido socialista instaba al gobierno vasco a modificar la normativa correspondiente a la asignación de perfiles lingüísticos en cada puesto de trabajo

con el objetivo de adecuar la valoración de su conocimiento a la realidad sociolingüística de las zonas de la comunidad autónoma del país vasco es el mismo punto que firmó el partido socialista como digo en el año dos mil dieciséis un poquito antes de hacer el vídeo de la campaña de septiembre de dos mil dieciséis de las autonómicas

también firmó entonces lo que no va a ser capaz de suscribir hoy que se adoptaran cuantas medidas para garantizar el principio de acceso en condiciones de igualdad en la provisión de puestos de trabajo y en las sustituciones

de perfiles lingüísticos bueno allá cada cual pero creo que los ciudadanos deben de saber también en esta materia dónde estamos cada uno

coherencia en defensa de la libertad individual del impulso del euskera pero desde luego impulsar

los derechos del acceso en este caso a la función pública como digo un derecho básico y un derecho

gracias señora presidenta buenas tardes señores y señoras parlamentarias feminismoarekin gauza asko ikasi ditut

cambio de rumbo en la exigencia desproporcionada del castellano en relación con otros méritos obligar a todo aspirante a un empleo público

sino también con muchos ciudadanos con el objeto de que el conocimiento del castellano no se convierta en un elemento determinante en el momento de acceder a un puesto es necesario revisar la exigencia del castellano y la excesiva valoración que se le otorga al castellano en relación con otros méritos

sencillo y por economía procesal

que todos nos hubiéramos remitido o le hubiéramos remitido al diario de sesiones para que supiera cuál es la postura de nuestro grupo en concreto y supiera

a lo que ustedes presentaron hace ahora casi tres años incluso podría haberse molestado

una pregunta parlamentaria al señor consejero que con sumo gusto no tengo ninguna duda que le hubiera puesto al día de cuáles son los avances y la situación

nos ha traído aquí ha hecho un copia y pega prácticamente de lo que presentaron hace unos años y nos lo ha justificado

a presentar la conclusión a la que he llegado es que han corrido mucho para que esa señora que sienta justamente detrás de usted no le gane la batalla y entre en un debate

especialmente y dentro de esa pelea han decidido ser los primeros en presentar esta iniciativa poniendo también

cuáles son sus verdaderas prioridades yo entiendo que la sociedad vasca no tiene como prioridad un debate de este tipo tiene cosas bastante más serias bastante más graves y bastante más urgentes a las que debemos atender y a las que debemos

egiteko habla usted señora garrido del principio de igualdad

a un principio de igualdad absolutamente puro no tendríamos que poner ningún tipo de requisito para que cualquier ciudadano se pudiera presentar a cualquier puesto de la administración pública eso sería un verdadero principio de igualdad pero entiendo que eso no sería ni eficiente ni se ajustaría a las necesidades que cada puesto de empleo público tendría

un principio de igualdad precisamente y curiosamente yo creo que no deben de confundir debates y aquí están confundiendo debates están introduciendo

para buscar una confrontación que no debe de existir esaten zenuen gobernuak daukan jarrera ez dio euskarari mesede egiten

de injusticia injusticia sería actuar de manera no conforme a la ley y no creo que el gobierno esté actuando de manera no conforme a la ley

hay unos letrados y hay unos servicios jurídicos que velan para que la acción del gobierno esté ajustada a esa ley y es lo que se ha venido haciendo

hablaba de la enmienda que hemos firmado los socialistas vascos y los nacionalistas vascos que por otra parte es muy similar a la que presentamos cuando presentó por primera

su propuesta entre otras cosas porque se sigue trabajando en lo que le y hablaba de viraje ya habló de viraje del partido socialista en el año dos mil dieciséis si es que parece que ha fusilado su discurso pero me da la sensación que esos virajes que nos

efectivamente en campaña electoral que después la acordamos entre los dos partidos

que sustentamos al gobierno que se tradujo en un acuerdo que ese acuerdo se ha vuelto a reeditar y que seguimos en la misma línea nosotros no hemos variado en absoluto nuestra opinión al respecto y por supuesto que en su momento exigimos la revisión

para qué la vamos a volver a exigir si ya se está realizando qué queremos seguir dando vueltas a algo que no tiene más vueltas me parece

que sería una pérdida de tiempo por tanto es evidente que se está haciendo lo que en su momento solicitamos y que ese trabajo por parte del gobierno

con un criterio de seriedad de objetividad absoluto que tendrá sus resultados y que cuando tengamos esos resultados creo que entonces sí será el momento de debatir

que emitir juicios sin tener conocimiento de lo que va a arrojar ese trabajo es un ejercicio absurdo que a lo único que nos lleva es a perder tiempo y a debatir sobre cuestiones

en absoluto ocupan el interés de la ciudadanía vasca eskerrik asko eskerrik asko

euskararekiko zuen jarrera birpentsatuko bazenute su planteamiento es o los mejores profesionales o los que saben euskera

como se ha dicho en iniciativas anteriores esto es un clásico y es como el almendro o las películas de

no hay que elegir entre una cosa y otra sorpresa señora garrido son compatibles y son complementarios además una formación completa se elegirá o tendrá más opciones

el conocimiento del euskera como a la vez que además de otros conocimientos que pueda tener

que el euskera es lengua cooficial de nuestro país y por ello

deben velar por su cumplimiento por que los derechos lingüísticos puedan ser

y al igual que se vela por la igualdad de género un gobierno democrático no se puede permitir no velar por la igualdad de dos lenguas cooficiales porque además existen unos derechos lingüísticos entre los que puede destacar el derecho a relacionarse el derecho de la ciudadanía vasca a relacionarse

con los poderes públicos con el sector público vasco en la lengua en la que elijan pero el colmo de su iniciativa es cuando dicen que su valoración la valoración del euskera

esta afirmación señora garrido es terrible no hay por dónde cogerla o sea que el servicio que se pueda dar en euskera es peor servicio el profesional que pueda dar el servicio en euskera es peor profesional el médico ertzaina

por favor yo también le rogaría igual que a los portavoces anteriores que dejen de arremeter contra el euskera y que dejen de arremeter contra las personas

como he dicho que han hecho un esfuerzo en acreditar esos perfiles lingüísticos para completar su formación para ser unos candidatos y candidatas más completas

o de la organización a la que entran pero también en beneficio pero sobre todo en beneficio de la ciudadanía a la que sirven

y también discriminan por supuesto los derechos lingüísticos de una parte muy importante de este país que por cierto derechos lingüísticos que tienen amparo constitucional usted dice que amparo constitucional el derecho de igualdad pero es que los derechos lingüísticos están amparados por la también por su constitución dicen que es una exigencia desproporcionada del euskera en relación con otros méritos y no es así es ajustada a la legalidad a la legalidad de la que nos hemos dotado en este parlamento entre ellas la ley la citada ley diez barra ochenta y dos que además

a la que este sector público sirve porque es que la sociedad vasca evoluciona y evoluciona la tendencia es a ser cada vez más bilingüe a ser cada vez más euskaldun

ya en ese periodo ha habido un proceso de normalización que ha sido gradual moderado y proporcional para nada agresivo y se puede decir que ha sido exitoso y ustedes igual harían bien también en evolucionar con la sociedad

les iría mejor se lo hemos dicho por activa y por pasiva

pero ustedes erre que erre vuelven a traer la iniciativa para a ver si hay suerte y cala ese mensaje esa manipulación

con la misma iniciativa y lo curioso es que en el primer pleno del inicio de la legislatura ustedes vienen con esta iniciativa es su prioridad con la que está cayendo en estos momentos de crisis es su prioridad es atacar al euskera al euskera

su prioridad es atacar a los profesionales que pueden acreditar un perfil lingüístico entiendo que en este momento ustedes tengan una cierta batalla política que tengan un complejo respecto al nuevo grupo que ha entrado en la cámara y que estén peleando

quién es el más auténtico pero lo que no es admisible es que en esa pelea

un mérito que primero hay que superar la fase de oposición como usted sabe

de concurso en la que se podrá valorar como mérito y en concreto usted dice es que se valora más bueno pues yo he sacado

de médicos de la última ope de osakidetza en las que la experiencia profesional se valora sesenta puntos

y el euskera el pe ele dos dieciocho puntos y el pe ele uno

no coincide para nada con lo que usted dice alguien también podría decir que valorar la experiencia

es injusto el de nuevo acceso también puede decir que el valorar sesenta puntos es injusto

no se le olvide también eso la parte sindical los representantes de los y las trabajadoras y bueno también en osakidetza que usted se centra y yo entiendo que esta iniciativa es general es de toda la función pública pero bueno usted se centra mucho en osakidetza

la atención presencial a la ciudadanía a la comunicación directa y esa comunicación también

debe ser precisa pero también clara y cercana y los pacientes y las pacientes tienen derecho a elegir la lengua en la que quieren relacionarse por lo tanto

cómodos y más en un momento tan importante en sus vidas o momentos delicados como cuando se

señoras y señores parlamentarios decirles que la proposición no de ley que presenta hoy el partido popular y ciudadanos

una buena noticia porque pone de manifiesto que no estoy sola en la legítima defensa de nuestra lengua la lengua común a todos los vascos la verdadera lengua del pueblo vasco que es el español sin embargo miembros del grupo popular y ciudadanos sí que es cierto que siento una cierta decepción

no hace falta ser un experto investigador para ver que se trata de una inicia calcada a la presentaron hace tres años en dos mil diecisiete

nosotros estamos aquí para defender la justicia y la igualdad de oportunidades en toda la nación española y para defender el hecho innegable de que en esta tierra se habla español

y es que salen así ustedes ante esta cámara derrotados y se ve en esta pobre defensa del español que hoy estamos contemplando españa se merece una defensa

se trata de decirlo alto y claro vivimos un proceso de persecución a cualquier atisbo de españolidad el euskera se ha convertido en una excusa para colocar a los suyos el euskera para el pnv y bildu es imposición

estamos además ante una discriminación que es absolutamente perniciosa para la sociedad vasca les daré un ejemplo de total actualidad sufrimos una escasez notable de personal sanitario a pesar de que pagamos los salarios más altos de españa

su obsesión psicopática por el euskera expulsa a los profesionales de alto nivel que se ven ninguneados por no hablar una lengua que es absolutamente irrelevante para el desempeño de sus oficios

etnolingüística pero es que los nacionalistas críticos y preocupados por las minorías salvo cuando les toca a ellos no quieren darse cuenta de que en álava

respeten la forma de vida alavesa que es a quien estoy representando yo hoy en esta cámara

una lengua cuya presencia en el país vasco no se justifica con una migración procedente del resto de españa de nuestros abuelos les recuerdo que es precisamente en álava el lugar en el que encontramos los restos más antiguos del castellano datan del siglo noveno dos siglos anteriores a las reliquias riojanas

dejen de dar lecciones señores euskaldunes y empiecen a estudiar la historia de mi tierra que es la historia de álava

de verdad creen señores de esta cámara que un nacido en gernika con el euskera como lengua tiene las mismas opciones educativas y oportunidades educativas que uno nacido en laguardia cuya lengua materna es el castellano o español muchas gracias

desde elkarrekin podemos izquierda unida consideramos el euskera como patrimonio y parte fundamental de la

como un derecho y también como una oportunidad una oportunidad de crear comunidad en clave inclusiva

para promover cambios sociales entendemos que toda persona tiene derecho a comunicarse relacionarse y ser atendida en la administración en cualquiera de los dos idiomas oficiales tenemos claro que no queremos políticas lingüísticas que excluyan a una parte de la ciudadanía

para que toda persona que quiera pueda conocer y aprender los idiomas oficiales y tengan la oportunidad de ello sin imposiciones ni condicionamientos esaten duzue

aldatzeko gaude nosotras como hemos dicho estamos a favor de una revisión de los perfiles lingüísticos que vayan en consonancia con la realidad sociolingüística pero también con las competencias comunicativas que requieran los puestos

al mismo tiempo que las trabajadoras puedan podamos desarrollar nuestras competencias lingüísticas con una política que lo acompañe y con los medios necesarios que fomenten la carrera profesional bueno hau guztia azalduta guk noski

se han tenido que ir lamentablemente de esta comunidad autónoma incluso otros no han podido venir en un escenario de déficit por ejemplo de personal sanitario por simplemente no acreditar un determinado nivel de euskera o no saber euskera yo los conozco

en el escenario en el que se mueve puede conocer estas cosas porque usted ha dicho que no considera que es una preocupación

pero aquí en vitoria sí es una preocupación de la ciudadanía vasca y mire lo decía el señor andueza y lo decía la señora larrauri que no es un tema de actualidad mire en un momento de crisis económica en el que la gente lo está pasando muy mal

y muchos conciudadanos nuestros que tienen la esperanza en las próximas ofertas públicas de empleo

los que jueguen y los que minusvaloren una iniciativa oportuna porque muchos ciudadanos vascos ven con expectativas el poder acceder a un empleo público y si quiera presentarse a una convocatoria pública y esas expectativas pueden verse frustradas claramente

y si no dígaselo a todos esos profesionales en el ámbito sanitario es muy palpable y si ustedes conocen un poco el medio y lo pueden saber que en el último año

cómo muchos profesionales sanitarios se tienen que dedicar

ese pl dos que da dieciocho puntos que señora larrauri no me diga los sesenta puntos de la experiencia o los veinte de la formación

sus estudios o cuando están de forma temporal prestando servicios

y mire la pena de todo esto y es que el sailburu kulturaren sailburua argi dago es que la propia política lingüística del gobierno vasco no ha dado resultados

primeros que ponen encima de la mesa que lamentan que después de todos los esfuerzos y económicos que se han hecho en el aprendizaje del euskera luego no se habla es que luego no se habla correlativamente a los esfuerzos

yo me he encontrado mucha gente con la que he coincidido en el euskaltegi me he dirigido en euskera a ellos

y es muy triste y para quien quiere llama el euskera y tiene además la suerte de saber las dos lenguas oficiales pero tiene la posibilidad de elegir

que no pueden elegir acceder o no pueden anhelar acceder a un empleo público porque simplemente el euskera se exige de forma excesiva en relación a otros méritos y como decía es muy triste encontrarte

al cabo de unos años y te dice no a mí háblame en castellano eta nola baina euskaltegian egon zinen nirekin no yo cuando fui al euskaltegui

y una vez que acredité el perfil lo metí en el cajón reflexione esa es la política lingüística que ustedes han seguido a lo largo de todos estos años que haya gente que simplemente va a aprender euskera

de euskera para poder tener un empleo público y eso es triste eso es muy triste

el tiempo fue el partido socialista cuando hizo ese vídeo no sé si querían ser originales perdió tiempo y dinero porque al final hicieron un vídeo que a la primera de cambio ustedes

es la misma que la anterior legislatura ustedes votaron que sí junto al partido popular y upyd la misma señor andueza ustedes me dirán dónde está el cambio

porque aquí el partido socialista desde luego ha abandonado la posición que tenía hace muchos años lamentablemente para el constitucionalismo y para muchos

señora martínez evidentemente no era de extrañar que ustedes tuvieran tanta coincidencia con el partido popular al fin y al cabo dice un refranero muy español

en cualquier caso la lengua de los españoles evidentemente

pero no es menos cierto que la lengua de los españoles también es el catalán

y también es el balear y también es el valenciano y también es el valenciano por qué no entre otras cosas porque está recogido en la constitución en los estatutos de autonomía otra cosa es que ustedes dentro de su mentalidad autoritaria

incluso tan añoradora del franquismo no quieran aceptarlo pero eso ya es un problema de ustedes no

la verdad es que no me ha sorprendido en absoluto su intervención me ha sorprendido el pequeño revival de unidad alavesa que nos ha

achacaba que la escasez de personal por ejemplo en sanidad en euskadi es por culpa del euskera mi pregunta es clara y directa ustedes

en los gobiernos por ejemplo de murcia de madrid o de andalucía que están teniendo

problemas en cuestiones de sanidad concretamente en andalucía donde ustedes tienen la responsabilidad porque ustedes forman

en ese caso la escasez de personal también es culpa del euskera

de porqué en andalucía tienen los servicios tan deteriorados que tienen con respecto a los que había cuando gobernábamos otros partidos

usted alegaba que ha habido muchos profesionales especialmente en el ámbito de la sanidad que no han podido venir a trabajar a euskadi no han podido acceder a un puesto

ha habido muy buenos profesionales que han venido de fuera de euskadi a los que no se les ha pedido ese requisito porque existía una necesidad

evidentemente de manera provisional pero bueno han cumplido con esos requisitos porque cuando hay algo que apremia y cuando hay una necesidad y existe una situación de urgencia este gobierno actúa igual que este gobierno han actuado otros pero no pongan esa excusa como baluarte en la defensa de sus

decirle que su iniciativa no es oportuna es oportunista que es muy distinto creo que hay que saber diferenciar es oportunista y es y ha venido acuciada

a la señora que ocupa el escaño que está justamente detrás de ustedes a mí sí me gustaría que les dijeran ustedes en base a lo que nos ha expuesto aquí

que tenemos en euskadi que son peores profesionales por saber euskera por qué ha venido a decir eso

como funcionarios como sanitarios como profesores es saber euskera y eso no es cierto euskadi cuenta con grandes profesionales que han accedido a su puesto de trabajo

que esos requisitos podemos revisarlos vale pero ustedes no se adelanten a lo que puede arrojar el trabajo que se está realizando desde el departamento que dirige el consejero zupiria por tanto yo le pediría que evolucione

una iniciativa que decía lo mismo que dice esta claro pero es que las circunstancias han cambiado es que me está hablando usted de hace por lo menos dos legislaturas evolucione

con estos señores en los cuales se establecía ya en la pasada legislatura

iniciativa que no se corresponde con la realidad que estamos viviendo en la actualidad señora

avanzada de mente abierta le pediría también que en estas cuestiones tenga usted una mirada un poquito más abierta y sobre todo evolucione de lo que llevaba usted presentando desde hace

porque es verdaderamente muy diferente para fortuna entre otras cosas de la ciudadanía vasca eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak larrauri

grupo mixto vox señora martínez su postura no es ninguna sorpresa

tiempos pasados en los que precisamente la libertad tampoco era la característica principal esa libertad que ustedes ahora quieren pretenden alegar

desde luego no en lo que se refiere al euskera eta

zuri gehiago esaterik y a la señora bueno el grupo pp ciudadanos señora garrido bueno pues a ver

tranquilo exitoso no ha habido ninguna revuelta en la calle dice que los profesionales

de euskadi que se marchan que se marchan bueno a ver la movilidad es

también se van profesionales y no creo que sea por el euskera la señora ayuso había prometido hace estamos viendo en la gestión otra cosa que hacen mezclar

con la política ideologizar la crisis del covid dice que faltan profesionales y que se van la culpa parece que también la tiene el euskera pues de madrid la

de buena gestión en la crisis del covid prometió profesionales en concreto médicos rastreadores pues no los ha conseguido no los ha conseguido y no creo que sea por el euskera no no sé es que la culpa de todo en este país la tiene el euskera el euskera y otras cosas típicas pero hombre un poquito de seriedad

y de rigor dice que luego que meten que la gente saca perfiles

que en las administraciones públicas vascas la obligatoriedad se supera o

en principio debería tener o sea que y luego no sé si usted está proponiendo también que entonces como no lo utilizan pues que entonces también se exija además de acreditarlo que lo usen en su trabajo interno o

pero entonces que hay que acreditarlo y además obligar a no sé es que no ese comentario la verdad que no y erre que erre otra vez con la discriminación la desproporción bueno como he dicho antes la discriminación y desproporción ustedes hacia los que a los candidatos que son que pueden ser más completos porque además tienen euskera y además en definitiva esto es un discurso pues caduco rancio

bien harían ustedes en entender mejor a esta sociedad y reconsiderar su postura con el euskera y es usted usted es peor parlamentaria por saber euskera usted es parlamentaria solo por saber euskera entiendo que no hombre no desprestigie el euskera y a los que tenemos como usted dice la suerte de saberlo y poder utilizarlo eta

quiero responder al señor andueza creo que no está usted bien documentado

precisamente porque nunca vamos al calor del poder como hacen ustedes eskerrik asko martínez andrea